jarriko dugu martxan la vacunación es la principal medida de prevención tanto individual como colectiva

la campaña de vacunación comenzará el próximo lunes veintitrés de octubre y se prolongará

tenemos dos objetivos por un lado preservar la salud individual de las personas pertenecientes a los grupos de riesgo y por otro lado también preservar la salud colectiva del resto de la población

la vacuna estará disponible en todos los centros de salud y ambulatorios de osakidetza

las personas con enfermedades crónicas las mujeres embarazadas

los y las profesionales de los ámbitos sanitario y social gure helburua zehatza

ha tomado las medidas para garantizar la vacunación tanto la vacunación como la seguridad jurídica del personal sanitario como todos los años el personal de enfermería será quien vacune contra la gripe al igual que administra las vacunas del calendario infantil para los niños y niñas

hemos dictado una orden estableciendo que la vacunación se realizará por indicación de la autoridad sanitaria en materia de salud pública ante el riesgo epidemiológico y con el fin de preservar la salud colectiva y de las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por la infección

esta decisión es acorde al acuerdo al cual contribuimos y adoptamos en la comisión de salud pública dependiente del consejo interterritorial el pasado veintiocho de septiembre quisiera lamentar el inmovilismo y la falta de responsabilidad del ministerio de sanidad servicios sociales e igualdad que desde hace ya veinticuatro meses mantiene sin modificación alguna el real decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince pese a conocer y reconocer

en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas desde el gobierno vasco mantenemos el recurso interpuesto hemos pedido reiteradamente su derogación o modificación

solicitamos a la ministra una convocatoria urgente y extraordinaria del consejo interterritorial sin que hasta la fecha se haya sustanciado en todo caso la campaña de vacunación se llevará a cabo gracias a las medidas adoptadas

a la profesionalidad responsabilidad y el compromiso de los y las profesionales tanto de enfermería como médicos que siempre han trabajado en beneficio de la salud de las personas que es y continuará siendo nuestro principal objetivo pertsonen osasuna da gure helburua horregatik

quizás hoy el acuerdo para un referéndum pactado no se vea cercano no sé cuánto tiempo será necesario pero tengo claro que puede posibilitar una solución definitiva a un conflicto de esta naturaleza estoy dispuesto a perseverar

una solución política y democrática ante situaciones similares en nuestro entorno pacto y no imposición pacto y democracia

unos a otros con regates en corto porque ninguna solución es mejor que una solución acordada eskerrik asko

egun on en las últimas semanas se ha producido un inédito cruce

en relación con una declaración unilateral de independencia que nunca se proclamó ni se votó bihar ministro kontseilua bildu egingo da

aplikatzeko beraz lehendakari jauna cuál es la posición de su coalición de gobierno ante la probable suspensión efectiva de la autonomía de cataluña y ante la apuesta
por vías dialogadas para resolver este conflicto político eskerrik asko martínez jauna erantzuteko

ante una posible mediación mire he dicho y reitero que no debe procederse en caso alguno a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

no se trataba de si se había procedido a la proclamación de independencia no se trataba de saber si se había procedido a la proclamación de independencia

no en cuanto a la posibilidad de una mediación lo importante es la voluntad de ambas partes de querer llegar a un acuerdo con voluntad
sin condiciones previas ni imposiciones creo que es posible eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

coincidimos en que la solución tiene que ser negociada y tiene que ser pactada en que

que se diga cómo se diga no es otra cosa que la suspensión de la autonomía de cataluña y que nuestra opinión además es una completa irresponsabilidad

y coincidimos en que la solución pasa como también ha dicho en algún momento entre otros por un referéndum legal pactado claro y con garantías guk uste dugu ere

bere deialditik hasita y aun reconociendo que coincidimos con los que usted hoy ha expresado la verdad es que tenemos algo más que la duda de si que lo hemos escuchado es la opinión del lehendakari

o la de su gobierno no sé si es más inexplicable que el psoe forme parte de un gobierno que dice estar en contra de la suspensión de la autonomía catalana

aceptando como socio un partido que aplaude cada actuación de rajoy aunque estas estén siendo rechazadas por las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos internacionales

amnistía internacional o el alto comisionado de derecho humanos de naciones unidas

estas cuestionan todas estas acciones que el psoe sigue apoyando y usted

va a permitirme que ponga en duda si es ética y políticamente aceptable ser un gobierno abanderado de la profundización de autogobierno y de modelos confederales

de un gobierno autoritario como el del partido popular y es que si he empezado diciéndole que uno tiene la duda

creíble la puesta de su gobierno por las soluciones dialogadas explíquenos señor lehendakari

por suplicación del ciento cincuenta y cinco se puede gobernar con el partido socialista que apoya se apoya en el partido popular ya en la suspensión de la autonomía catalana de verdad que queremos entender toda esta cuestión pero es difícil por lo que

de este partido del psoe en la radio de su propio gobierno

bukatzeko azkenean beno ba jakin nahi dugu cómo va a ser creíble su apuesta por la profundización del autogobierno

y por soluciones políticas para cataluña lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor martínez yo le permito cómo no
usted lo ha dicho así en albergar todas las dudas que pueda tener en relación a lo que pueda ser la coalición de

ahora es necesario que se aclare usted sus propias dudas en relación a que tenemos un programa de gobierno y es lo que nos une

podemos con el partido socialista obrero español en otras comunidades autónomas en el estado español en cualquier caso señor martínez yo he propuesto mirar hacia adelante tenemos que mirar al presente y al futuro el presente nos dice que encima de la mesa no hay una declaración de independencia

el presente nos dice que la peor de las soluciones es aplicar un artículo de la constitución que posibilita la intervención de una comunidad autónoma sabemos cómo empieza no cómo puede terminar sí sabemos que no va a solucionar el problema

diálogo con realismo dialogo sin condiciones previas y sin humillaciones diálogo con voluntad de acuerdo y con plena conciencia

de las consecuencias de las decisiones que se adopten por unos y por otros como responsables políticos debemos proponer soluciones políticas

y en este sentido hasta ahora he citado los modelos de quebec canada o reino unido escocia como una referencia como una referencia nos corresponde sobre todo un compromiso con nuestra propia realidad y en este sentido insisto en la oportunidad de avanzar en un punto de encuentro en la ponencia de autogobierno en la que por primera vez

nuestro objetivo compartido debe ser convertir la vía vasca la vía vasca en nuestro propio modelo de resolución de solución y en una referencia la bilateralidad también puede ser una referencia para el resto vamos a seguir trabajando por el acuerdo yo creo que esto es lo importante trabajar por el acuerdo

señor consejero la actividad comercial en euskadi tiene una indudable relevancia en términos de creación de riqueza y de generación de empleo el sector comercial vasco se enfrenta a cambios estructurales profundos se enfrenta

propiciados por las nuevas tecnologías y por la globalización de los mercados su departamento señor retortillo trabaja acompañando al sector con programas de ayudas formación

tiene que tener definidas sus herramientas de competitividad y de afianzamiento

son fundamentales para conectar a los jóvenes emprendedores con el sector y para fomentar el relevo generacional de modo que el comercio vasco pueda reinventarse

transmisión empresarial preparación y formación son elementos básicos para que el sector del comercio local pueda contar con los y las mejores profesionales

y adecuarla a las necesidades de los nuevos tiempos y los nuevos hábitos de consumo en el acuerdo de gobierno los socialistas nos comprometimos a apoyar el comercio local como un elemento fundamental para la consolidación del empleo

dentro del eje un crecimiento sólido con más y mejor empleo y dentro del apartado promoción del turismo comercio local y consumo responsable se encuentra el compromiso número treinta y uno titulado fomento de la competitividad del sector comercial vasco entre las iniciativas de este compromiso

como elemento fundamental para la consolidación del empleo y de la dinamización de los pueblos y ciudades gestionando así mismo de forma eficiente los espacios urbanos

y consumo está trabajando llevando a cabo diversas acciones con la finalidad de cumplir con el compromiso adquirido por el gobierno de impulsar el modelo comercial vasco un comercio que además de desarrollado será eficiente y competitivo nuestras políticas deben estar dirigidas a la generación de riqueza y a la creación de empleo estable y empleo de calidad y todo ello en un escenario como el actual

y más profesionalizado con importantes cambios en las pautas de consumo y en el que la excelencia y la calidad en el producto y en el servicio son cada vez más determinantes en la elección de la compra y por lo tanto en la consecución de resultados y es preciso seguir realizando acciones destinadas

a un sector como el del comercio minorista que durante la crisis se enfrentó a graves dificultades y a muchísimas pérdidas de empleo pero para poder plantear nuevas medidas nuevas acciones diseñar políticas eficaces es preciso tener un diagnóstico claro de la situación actual del sector y por eso le preguntamos señor consejero

del comercio local en euskadi gracias eskerrik asko corcuera andrea retortillo jauna

como usted sabe en este departamento optamos por la gestión basada en información

no percepciones esa es la diferencia entre hacer política para conseguir resultados que redunden en beneficio de la ciudadanía o confiar todo a las sensaciones a las impresiones y a dar bandazos en función del criterio que marque la agenda de cada semana por eso me parece muy oportuna su pregunta acerca de la situación actual del comercio en euskadi por eso y porque la ciudadanía merece que en este privilegiado espacio de la representación política además de los ejercicios de esgrima parlamentaria en ocasiones incluso tramposos ejercicios de esgrima parlamentaria

de cuáles son las realidades de los sectores más relevantes del país en el departamento hemos realizado una radiografía y un seguimiento en profundidad del sector del comercio local en euskadi tenemos un total de cuarenta y uno mil seiscientos sesenta y nueve establecimientos comerciales

en euskadi disponemos de una oferta comercial claramente superior

europeos en cuanto a números de establecimientos por habitantes la tasa de densidad comercial en euskadi es del doce coma tres por ciento dos coma cinco puntos por encima de la tasa

y más de cuatro puntos superior a la europea que está en ocho

los empleos que garantiza el sector comercial en la actualidad el comercio vasco emplea

para la economía vasca como es el sector industrial

el noventa y siete por ciento de los puestos de trabajo que genera el sector comercial corresponde a empresas de menos de diez trabajadores su actividad supone para el producto interior

que se inyectan a la economía de euskadi cerca del once por ciento del total el empleo en los comercios vascos sufrió descensos continuos desde el comienzo de la crisis hasta dos mil trece

el comercio vasco ha incrementado los niveles de afiliación a la seguridad social año a año el sector en general ha tenido una caída del empleo superior al diez por ciento

ha comenzado a remontar en dos mil quince y dos mil dieciséis a pesar de que el año dos mil doce

ha ido recuperándose y en la actualidad el comercio en su conjunto tiene unas ventas

la caída del número de comercios existentes es una tendencia que se ha ralentizado en dos mil catorce esa recuperación aunque marca una tendencia positiva no deja

son disruptivos y con recursos que vienen dados por su tamaño

la venta por internet de todo tipo de productos está siendo

y en esta liga no importan las fronteras a efectos de ser una amenaza no importa el tamaño ni que el conglomerado tenga sede en europa en estados unidos o en asia

de esas compras digitales es el mismo los cambios que además producen estas empresas en los hábitos de los consumidores vascos son similares a las de otros lugares por más que nuestro tejido comercial sea en algunos aspectos diferente estamos desarrollando un plan estratégico en el departamento para hacer frente también a esa amenaza que podrá visualizarse pronto

con medidas que contribuyan a recuperar nuestro importantísimo sector comercial

yo entiendo que en política a veces es una decisión consciente y no fácil no hacer nada

entiendo que usted a veces es más apreciado por lo que no hace que por lo que consigue llevar adelante en todo caso ese tipo de liderazgo tan prudente pues preocupa en la medida en que

sobre todo cuando son ustedes mismos los que han comprometido unas reformas determinadas no es que se lo haya dicho otro sino que ustedes

la reforma de la política fiscal y financiera de manera que usted se autoemplazó y nos dijo que iban a plantear la reforma

la actualización de la normativa fiscal por tanto este era el compromiso que tenía su gobierno y lo que querían

un compromiso con su socio de gobierno y también nos dijeron que haríamos aquí un pleno monográfico

a cualquier modificación que se hiciera en las juntas generales por tanto había asumido usted una responsabilidad directa en impulsar esa reforma estamos a dos semanas de que se presenten los presupuestos

que primero el consejero nos dijo que iba a ser estructural y de fondo y que últimamente su socio de gobierno nos dice que se va a quedar en nada que se va a quedar solamente en unos pequeños retoques

es bueno tocar el tipo nominal del impuesto de sociedades en eso además coincidimos con miembros cualificados de su partido con importantes responsabilidades institucionales entendemos

se pidió un esfuerzo a los ciudadanos para mantener

ahora que las cosas van bien y que la recaudación crece a un ritmo del diez por ciento de devolver ese esfuerzo a los ciudadanos el que se le pidió en el tiempo

hubiera una reforma fiscal y que hubiera una reforma fiscal en esa dirección y que hubiera una posición

que había planteado cuál es su posición y si nos va a hacer finalmente algún planteamiento en este escenario de presentación de presupuestos definición de la política de gasto sobre la política de ingreso
de las administraciones vascas para el próximo año eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor alonso entiendo que usted haya hecho la introducción a su exposición porque está seguro usted en debido de esa cultura de no hacer nada también de la responsabilidad del gobierno español

ante lo que es el fondo de la cuestión es que no voy a especular

y estos principios son responsabilidad certidumbre y confianza la actitud del gobierno se centra en dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de euskadi desde la responsabilidad hemos analizado

de la reforma fiscal tras tres años de aplicación tal y como establecía nuestro programa eso es lo que establecía nuestro programa hemos realizado propuestas concretas de mejora

garantizar tanto los servicios públicos como la competitividad empresarial desde el principio de responsabilidad hemos evitado convertir el tema fiscal

incluso en esta misma institución todavía en el tiempo en el que estamos de negociación política sobre la cuestión mi postura es coherente con el principio de certidumbre y está escrita en el programa del gobierno impulsar desde el órgano de coordinación tributaria

de la normativa fiscal precisa para incentivar la actividad económica la innovación y el empleo y para salvaguardar las políticas sociales y los servicios públicos esenciales

y garantizar que el impuesto de sociedades no perjudique la competitividad del tejido empresarial vasco las propuestas a las que usted alude señor alonso sobre el conjunto del sistema impositivo no sobre una figura determinada u otras sobre el conjunto del sistema impositivo que están sobre la mesa mejora a mi modo de entender la normativa en vigor con la doble finalidad

así como garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos estas medidas lo sabe usted señor alonso se encuentran en el ámbito de la negociación política y por lo tanto hoy mi mensaje es de confianza y de apelación al consenso en esa negociación política

eso está encima de la mesa pero debe ser encima de su mesa porque de la negociación política pero no una negociación política de la que nosotros tengamos noticia

en los que la mayoría es necesaria pero en este tipo de acuerdo tan importante en materia fiscal no parece que se nos considere y no parece tampoco que nadie sepa nada

los parlamentos nacieron para hablar de impuestos y por tanto es razonable también que haya transparencia y que usted defina claramente cuál es su posición y que usted dé alguna garantía de que esta no va a ser nuevamente una oportunidad perdida y que usted nos diga que efectivamente con su socio no puede bajar el impuesto de sociedades porque el partido socialista se opone

su socio de gobierno y entonces que nos diga qué tipo de liderazgo puede ejercer usted dentro del gobierno con las diputaciones forales y también con su propio socio de gobierno porque la impresión que hay en los medios en la calle en todos nosotros

adelante una reforma fiscal porque su socio de gobierno no les deja esa es la impresión y por tanto yo le pido mayor claridad

cuándo va a presentar usted las líneas de la política fiscal cuándo va a convocar el pleno monográfico que tiene prometido y cuándo va a venir a aquí a explicarnos en detalle no con palabras huecas
que es lo que va a ocurrir eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

me llama la atención me llama la atención las incongruencias cuando menos

primero yo no soy el que convoco los plenos y segundo que lo que es la política fiscal es competencia de las juntas generales de los territorios históricos

que si hay una negociación será en el ámbito de lo que corresponde a las juntas generales de los territorios

a decir que no hay ninguna negociación o que ustedes no saben nada cuando la negociación estaba depositada en lo que es el ámbito competencial

y sugiere además también divergencias en las posiciones que defendemos distintos representantes o responsables institucionales yo voy a insistir en el principio de confianza confianza

que mejore y actualice el acuerdo vigente alcanzado entre otros con el partido popular confianza en un escenario de ingresos fiscales aprobado en el consejo vasco de finanzas con el acuerdo unánime de todas las instituciones confianza en un escenario que conjuga

y seguir mejorando la competitividad empresarial para crear más empleo responsabilidad certidumbre y confianza esto es lo que más valoro eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

jasotzen zen para muchos chicos los deportes de contacto físico fútbol rugby etcétera pueden no solo ser divertidos sino que de hecho pone la base para una duradera amistad para las chicas

no construye amistades más bien las destruye en los colegios mixtos ambos modos de vivir la agresividad

con la coeducación como principio en coherencia con los preceptos emanados de la ley cuatro barra dos mil cinco para la igualdad de mujeres y hombres y del decreto

apostando por una educación que debe contribuir al desarrollo integral de la persona

los centros educativos según lo previsto en la normativa de admisión del alumnado deben promover la igualdad de oportunidades en el acceso al centro educativo

ofreciendo las mismas oportunidades educativas a todos los niños niñas y adolescentes

que apoyen el proceso educativo y prevengan el riesgo del fracaso escolar en favor de quienes presenten desventajas económicas sociales culturales o personales

surge de la perplejidad la impotencia y preocupación que nos ha llegado de tantas personas en especial de tantas mujeres

de violencias machistas que hemos conocido en las últimas semanas nos hacemos eco de esta preocupación y la traemos aquí con el objetivo de que todas y todos

podamos impulsar las medidas que sean necesarias para redoblar esfuerzos porque las que hay son escasas queremos un parlamento y un gobierno que den señales claras inequívocas más allá de declaraciones y reacciones de condena cuando suceden feminicidios más allá de los días señalados como son el ocho de marzo y el veinticinco de noviembre

según datos de diferentes instituciones han aumentado las denuncias el número de denuncias por violencias machistas

el departamento de seguridad y la fiscalía además las últimas semanas estamos asistiendo a un creciente número

con las que nos desayunamos día sí y día también ha aumentado el número de denuncias por violencia de género ejercidas por pareja

por violencia ejercida por desconocidos como ejemplo tenemos las fiestas locales

a toda la historia de luchas reivindicaciones y propuestas de movimientos de mujeres y feministas también reconocemos que algunas políticas han sido importantes

sin embargo las instituciones vascas tienen que estar preparadas no solo para sensibilizar y concienciar también para hacer una intervención integral de prevención detección precoz protección y reparación pero para esto para todo esto es necesario imprescindible que todo el gobierno vasco todo todas las instituciones a todos los niveles se comprometan y asignen recursos señor urkullu queremos una

es avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades y resultados absolutamente en todos los ámbitos de la vida

de los presupuestos del tratamiento o mejor dicho de la omisión que se hace de la igualdad y la erradicación de las violencias machistas que en algunos departamentos en algunos planes en las diferentes instancias

desde elkarrekin podemos consideramos que esta vulneración sistemática de los derechos de la mitad de la población no tiene lugar el lugar de prioridad que le corresponde en este parlamento y en este gobierno

en el total del presupuesto del gobierno vasco y por consiguiente unas políticas sectoriales insuficientes y en cuanto a la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas públicas estamos lejos muy lejos de ese horizonte señor urkullu mire

cuando preguntábamos y cuestionábamos el pobre presupuesto de emakunde

la inversión en materia de igualdad del gobierno es en torno a los veintidós millónes de euros

señor lehendakari estos veintidós millónes son el cero coma cinco por ciento del presupuesto total repito en materia de igualdad

de este gobierno es el cero coma cinco por ciento de presupuesto total no olvidemos

proviene en gran medida del estado español para las ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia por parte de pareja

este es según el propio gobierno vasco el grueso de presupuesto para igualdad y violencia cero coma cinco por ciento del presupuesto total magnífico

en la asignación y distribución de los recursos es donde podemos comprobar realmente cuál es la prioridad que le dan

cero coma cinco por ciento conocemos las políticas que se han llevado a cabo hasta el momento esperamos que no nos haga un relato pormenorizado de lo que ya sabemos y nos cuente algo nuevo algo nuevo ante el aumento constante del número de denuncias ante los gravísimos episodios de violencia machista de los últimos día incluidos dos feminicidios al que tenemos que sumar

años en mayo y al feminicidio cometido por un bilbaíno en ecuador

más recursos repito más recursos prioridad y compromiso real de todo el gobierno vasco de todo el gobierno vasco

del último mes esperamos que su gobierno proponga más medidas más recursos prioridad y compromiso real señor

días creemos que nos presente las nuevas medidas que este gobierno va a llevar a cabo queremos que nos presente las nuevas previsiones de este gobierno para intentar

ni ningún tipo de medida que se salga de lo ya establecido están pasando cosas muy graves en euskadi señor urkullu y no vemos que se estén tomando medidas

es por ello que le preguntamos señor urkullu qué nuevas medidas tiene previstas el gobierno vasco contra las violencias machistas porque las que existen a la vista de los datos

señora arana comienzo por reconocer con absoluta claridad la gravedad de este problema

y me consta además que la preocupación ante esta cuestión es compartida como usted ha dicho que comparte el objetivo ahora bien permítame preguntarle cree usted que es

y la finalidad de este gobierno poner fin a esta situación poner fin a lo que pueda ser las agresiones machistas es ese el cometido

o es otro el objetivo el de un gobierno en una reivindicación absolutamente compartida como es la transversalización de las políticas de igualdad que nos corresponde a nosotros como gobierno mire he reconocido en esta cámara hace solo un mes que un solo caso de violencia de género es suficiente y es grave y he reiterado el compromiso de nuestro gobierno para afrontar esta lacra social para afrontarla

el gobierno ha demostrado capacidad de interlocución y escucha para ir incorporando todas aquellas medidas que pueden contribuir a avanzar en el objetivo social de la igualdad y en la erradicación de la violencia machista incorporar todas las medidas que se han ido proponiendo además de las que haya podido implementar el propio gobierno en sí es necesario perseverar y aplicar un conjunto de medidas diversas mantenidas en el tiempo que abarquen todos los planos

detección atención protección y también mayor sensibilización social nos encontramos sí ante una vulneración de derechos que requiere una respuesta integral y coordinada

sino que tiene que ser permanente en el tiempo y actuar sobre el origen mismo de la violencia en los principios de la ley vasca para la igualdad y del sexto plan compartimos que la raíz del problema se encuentra en la desigualdad entre mujeres y hombres así

el gobierno vasco está siguiendo el camino y la estrategia marcada por los organismos internacionales en sus correspondientes planes de acción tomamos en consideración así la plataforma de acción de beijing de mil novecientos noventa y cinco

entre otras y siguiendo estas referencias el gobierno y el conjunto de las instituciones vascas estamos abordando el fenómeno de la violencia contra las mujeres en el contexto del problema global de la desigualdad este planteamiento responde a la premisa de que la violencia contra las mujeres es una manifestación probablemente la más sangrante

la prevención y la erradicación de dicha violencia solo será posible señora arana si se promueve la igualdad de mujeres y hombres de una forma integral y multisectorial esta es en realidad la lógica a la que responde la propia ley cuatro barra dos mil cinco que aprobamos en este parlamento insisto porque no me ha escuchado la prevención y la erradicación de dicha violencia solo será posible si se promueve

las instituciones y no solamente el gobierno las instituciones estamos trabajando para ofrecer cada vez

coordinada e integral a las mujeres víctimas y junto a esto no perdemos de vista la importancia así y lo tengo que subrayar de la sensibilización y de la prevención

si no actuamos en su origen prevención sensibilización coordinación acción judicial protección a las víctimas

este es el camino y estamos trabajando en todas sus etapas mire señora arana nuestra determinación es seguir trabajando con todas las medidas que hemos puesto en marcha

las ayudas económicas a mujeres víctimas el servicio de atención telefónica veinticuatro horas protocolos de atención sanitaria medidas de seguridad formación a profesionales además de la prevención y de la sensibilización pero me voy a detener

además de diferentes campañas dirigidas a la sociedad en general trabajamos de manera específica a través de tres programas nahiko beldur barik

en el programa coeducativo nahiko para la igualdad el respecto y la no violencia participan tres mil niños y niñas de primaria cada curso tres mil cada curso en el programa beldur barik han participado

presentando sus trabajos en la iniciativa gizonduz para promover la concienciación la participación y la implicación de los hombres en pro de la igualdad han participado un total de

desde dos mil nueve tenemos que mejorar sí y vamos a seguir trabajando para ello sabemos que los datos relativos a la violencia contra las mujeres

comparativos del año dos mil dieciséis dos mil diecisiete en los ámbitos que usted ha mencionado como también las violencias que han generado muerte desde el año dos mil doce hasta este año los tengo

vamos a seguir trabajando desde ese reconocimiento de que los datos relativos a la violencia contra las mujeres representan

somos conscientes de que en las últimas décadas existe una mayor sensibilización de la sociedad lo que contribuye a que afloren casos que anteriormente podrían permanecer ocultos o podrían haber permanecido ocultos

que los casos se denuncien no podemos obviar que este era un asunto del ámbito estrictamente privado hasta hace relativamente poco hoy aunque queda camino por recorrer creo que podemos decir que la violencia contra las mujeres

que más allá de los recursos económicos presupuestarios está en la agenda política es un problema que está en la agenda política el hecho de que se interpongan por ejemplo más denuncias no significa necesariamente necesariamente que los casos aumente y digo necesariamente

sino que puede ser indicativo de que las sensibilización social está calando y que las mujeres ya no están dispuestas a pasar por alto situaciones que en otros momentos no se denunciaba y ahora sí aflorar los casos y denunciarlos está unido

y preventiva evidentemente con ello yo como lehendakari y el gobierno no queremos minimizar los casos existentes y tampoco

vuelvo a reiterar que el hecho de que exista un solo caso uno solo es motivo para continuar trabajando

prevención atención protección y sensibilización social sin eludir la obligación y la responsabilidad de los poderes públicos considero que solo desde ese compromiso compartido que usted ha mostrado también señora arana y compromiso compartido de toda la sociedad podremos hacer frente a este problema estructural más allá de lo que puedan ser

que van más allá de lo que son las partidas concretas sino que se incluyen también en los programas en los planes que tiene cada uno de los departamentos siendo que este es un aspecto

eskerrik asko señor urkullu usted ha dicho sí

es su cometido crear leyes crear recursos crear medidas para que esta desigualdad cambie es su responsabilidad poner las medidas educativas suficientes para desde el inicio de la etapa educativa de los niños y niñas se empiece a trabajar este tema es su compromiso y el de su gobierno

mire en la últimas semanas hemos asistido a un creciente número de graves episodios le voy a decir veinte días en veinte días todas estas noticias donostia una mujer presenta una denuncia por una agresión sexual bilbao la ertzaina detiene a un individuo de veintiséis años por agredir sexualmente a una mujer que conoció

a una menor arrigorriaga una joven es abordada por un desconocido

que se produjeron en sus calles una ertzaina fuera de servicio recoge a una mujer agredida etcétera etcétera más de treinta noticias sobre este tema

le parece a usted que esto no debería ser una cuestión que provoque que ustedes empiecen a trabajar y hagan medidas

no quiero ni pensar lo que no se ve de verdad que esto no es un problema de usted y de su gobierno

de emakunde es suficiente de los diez organismos autónomos

es el antepenúltimo en el ranking el antepenúltimo a usted le parece que eso tiene la prioridad suficiente para poder trabajar para erradicar las violencias entre hombre y mujeres las violencias machistas perdón eso le parece usted

y que por ello es importante abordar las desigualdades que se dan por ejemplo en el mercado laboral la economía y el desarrollo económico pues mire señor urkullu las mujeres no acceden en igualdad de oportunidades al mercado laboral

una vulneración de sus derechos de nuestros derechos y un despilfarro del capital productivo de las mujeres por ejemplo académicamente presentan mayores niveles de cualificación y mejor rendimientos pero la tasa

la brecha de género se incrementa a medida que se va teniendo más descendencia cuando no se tienen hijos

las mujeres representan el ochenta por ciento de las personas que trabajan a tiempo parcial

es necesario e imprescindible considerar y contar con estos datos a la hora de diseñar las políticas de desarrollo

sin embargo como ejemplo de la omisión y de la falta de la apuesta política

hemos asistido a la no aprobación repito no aprobación de propuestas para incorporar el principio de igualdad en un clúster de la formación universitaria en ingeniería

me puede decir algo respecto a este tema por qué no se ha incluido

la economía es clave para la igualdad señor urkullu la tecnología y la industria son sectores estratégicos en el desarrollo económico de euskadi y se está dejando fuera al cincuenta por ciento de la población

el informe dos mil dieciséis sobre maltrato entre iguales destaca que hay un doce coma dos por ciento del alumnado de educación primaria que dice que se excluye por ser chica en el informe sobre igualdad de género en educación de primaria y eso de se ha detectado que solo un cuarenta y seis por ciento de los planes de primaria un cuarenta y seis por ciento abordan la detección

un cincuenta y cinco por ciento aborda estos temas solo en actividades puntuales a esto le parece a usted que es estar trabajando para erradicar la violencias machistas

no olvidemos que el sistema educativo es el espejo de nuestra sociedad señor urkullu

de forma constructiva pensamiento crítico y transformar valores como ve

ahora mismo incremente el presupuesto para erradicar las violencias machistas cuente con nosotras vamos a apoyar y a acompañar siempre todos los procesos orientados a poner las políticas de igualdad en el lugar de prioridad que corresponde pero también vamos a ser exigentes y vamos a señalar cada vez que se incumple y no serán los presupuestos suficientes

para abordar esta situación que es muy grave señor urkullu y vamos muy tarde eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora arana me provoca curiosidad el asentimiento que usted refleja cuando yo le ofrezco las explicaciones con lo que son sus gestos desde el escaño y el tono que utiliza cuando sale a tribuna y el discurso que utiliza cuando sale a tribuna me provoca una cierta curiosidad señora arana

en lo que ha dicho que es el fin de lo que tiene que conseguir como objetivo este gobierno y lo que ha dicho en su segunda intervención cuál es el fin el de terminar con la

o el fin es que este gobierno tiene que terminar con la violencia machista y con las muertes de la violencia machista señora arana y aclárese también en relación a lo que yo le he respondido en la primera intervención mire yo no voy a utilizar su tono demagógico su tono demagógico entre lo que son los datos entre lo que es la utilización de los datos para lo que es la reivindicación de un mayor presupuesto para lo que es el ámbito de las políticas de desigualdad

nada que ver señora arana sino con lo que es

caracteriza lo que es su utilización también de este tema como tan grave que es mire como sabe en euskadi hemos normativizado la respuesta

que regula la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres en coordinación con otras leyes ese es

este es un problema estructural multidimensional y global que se produce en mayor o menor escala en todos los rincones del planeta y atajar este problema

y con innumerables numerosos e innumerables diría yo aristas

erradicarla de un día para otro y que un gobierno no pueda

exclusivo el de erradicar esta cuestión atajar este problema estructural demanda actuar en todos los ámbitos tal y como recomienda el convenio europeo para prevenir y combatir la violencia

konpromisoa lortzea egiturazko arazo honi aurre egiteko me parece necesario remarcar que no partimos de cero que euskadi fue pionera

incluyendo un capítulo específico para hacer frente a la violencia contra las mujeres

el vínculo entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres sin duda nos queda camino por recorrer pero es justo reconocer el trabajo realizado y no me refiero solo a los ámbitos institucionales gobierno diputaciones y ayuntamientos también a las asociaciones y movimientos de mujeres y en definitiva

a seguir reforzando las medidas puestas en marcha y plantear nuevas iniciativas y en este sentido el gobierno ha incluido en el calendario legislativo en el programa legislativo

de lograr la erradicación de la lacra social que supone la violencia contra las mujeres a este fin tomamos en consideración la necesidad de adecuarnos a los nuevos

por lo tanto también a los estándares europeos de derechos humanos principalmente el convenio de estambul así como también a las nuevas leyes de protección a la infancia y a la adolescencia

en el proceso de elaboración de esta nueva propuesta normativa que afectará a todos y no será solamente objetivo de un gobierno

la ley del año dos mil cinco señora arana en el proceso de elaboración de esa propuesta normativa de erradicación de la violencia contra las mujeres estamos abiertos

y de todas las asociaciones implicadas y mi deseo como lehendakari precisamente por la gravedad de este tema es lograr el máximo consenso posible porque en definitiva toda la sociedad vasca es partícipe de este objetivo que es de país eskerrik asko

cuál es la opinión de gobierno vasco sobre la construcción de un muro en el puerto de bilbao momentuz

guanche andrea nos encontramos ante una realidad de especial sensibilidad

yo desde luego me decanto por garantizar la dignidad la seguridad los derechos y los deberes de todas y cada una de las personas de todas

en un lugar en el que se produce actividad de mercancías y en una infraestructura crítica y hablamos de ofrecer condiciones dignas de vida a unas personas que están huyendo de una situación

de persecución y de miedo pero vayamos por partes estamos trabajando en una comisión interinstitucional diputación gobierno vasco ayuntamientos implicados elementos de seguridad

en primer lugar la coordinación decía institucional la asistencia humanitaria informando asesorando a todas las personas que llegan con las opciones legales que se les ofrecen en la prevención considerando el alto riesgo que corren esas personas

un tráfico importante de mercancías la seguridad en el ámbito de los municipios en los que se están moviendo y en quinto lugar y no menos importante la convivencia

de todos los que estamos viviendo en estos momentos aquí estamos trabajando desde la máxima responsabilidad la máxima sensibilidad pero también desde luego

todas y cada una de las instituciones en esa comisión interinstitucional

sobre todo porque nosotras lo que queríamos preguntar

pero no me ha respondido a la pregunta harresi bat eraikitzea aberrantea da aberrantea da bai euskadin bai edozein lekutan

está haciendo algunas cosas o más bien está diciendo que hace algunas cosas porque de momento no estamos viendo situaciones concretas pero voy a preguntar de una manera explícita qué han hecho

en el consejo de dirección del puerto cómo se liga la construcción de un muro destinado a que las personas no puedan pasar

por ejemplo los valores del puerto los valores de confianza compromiso los valores de integridad los valores de compromiso con las personas es coherente es coherente también esto

hemos leído titulares de prensa que dicen cosas como el muro de la vergüenza se está construyendo en bilbao bilbao entra en el penoso club de las ciudades con muro como el que separará aún más la américa de trump de méxico como el de ceuta con marruecos

el reino unido paga la construcción de un muro también de cuatro metros de altura y un kilómetro a base de hormigón resbaladizo para evitar como en el puerto de bilbao

el espíritu de donald trump está en el puerto de bilbao que va a pasar cuando este muro esté construido porque a mí la respuesta que usted me ha dado hoy no me parece que pidan y ofrezcan ningún compromiso me parece que miran a otro lado

señores y señoras del gobierno euskadi es una tierra solidaria es una tierra de acogida es una tierra que emigró es una tierra que esto

es una tierra en la que no queremos armas en el puerto es una tierra en la que no queremos muertos en los muros es una tierra que no quiere y sobre todo no quiere un gobierno que lo permita mirando hacia otro lado van ustedes en pro de ese compromiso a trasladar al partido popular

que digan que no a la construcción de un muro que simbólicamente nos aleja de los derechos humanos y nos acerca a la impunidad van ustedes a hacer eso

y el verdadero compromiso de este gobierno con los derechos humanos de todas las personas es un deber que tengamos estándares altos de derechos humanos es un deber darse cuenta y reconocer públicamente que euskadi ya es una tierra de tránsito

como siempre hemos dicho cuentan con el compromiso de elkarrekin podemos para hacer esto pero para hacerlo de verdad

accesorio o no primordial para nosotras los derechos humanos están en primera línea y la construcción de este muro nos aleja mucho

pero demagogias no vamos a decir la verdad demagogia no el puerto además de otras cosas además de otros aspectos es una infraestructura crítica donde

sean de una nacionalidad de otra sea usted o sea yo está prohibido y hay que asegurar la seguridad de las personas que están trabajando en el puerto

en ese ámbito existe además una exigencia legal por la cual hay que trabajar

la seguridad de una infraestructura crítica como es el puerto con un muro construido en determinado lugar entre dos ciudades son dos aspectos absolutamente diferentes ahora

y este país no respeta ni trabaja por los derechos humanos cuando sabe usted perfectamente que somos ejemplo de respeto de derechos humanos pero no quiera a través de esa demagogia que ha realizado en esta tribuna a todos los ciudadanos y ciudadanas en esa comisión interinstitucional se trabajan todos y cada uno de los ámbitos que le he citado cinco concretamente todas las instituciones cear y cruz roja trabajando por los derechos

que llegan a euskadi luego no confunda las cosas ni nos quiera confundir a todos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako bederatzigarren puntua

erantzuna bastante grave señor erkoreka porque usted es presidente de una comisión

nahiko argia beraz y no se confundan porque esto no es una cuestión solo de cumplimiento del código ético o no sino tiene un trasfondo político muy importante señor erkoreka

nosotras no tenemos ni mucho menos nada contra

como buen replicante en las políticas de ferraz a mí lo preocupante me parece que le mantengan como alto cargo y que haya

porque eso es lo realmente preocupante preocupante

que aboguen por la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco que avalen la intervención de las autonomías y que además lo consideren una medida equilibrada preocupante es

de un partido que dice defender la plurinacionalidad pero que aplica el artículo ciento cincuenta y cinco a las primeras de cambio preocupante

la califican como una oferta de diálogo tramposa desde el inicio preocupante es que mantengan a un alto cargo en su gobierno que dice si se sigue así en adelante no creo que pudiera haber otra vía justificando así el posible encarcelamiento del presidente puigdemont

preocupante es que olviden ustedes que no hace tanto tiempo también se intervino la autonomía vasca se intervino

si no de qué otra manera hubiesen gobernado aquí el partido socialista y el partido popular preocupante

por lo tanto señor erkoreka lo único que lo solicitamos es que queremos hechos queremos hechos queremos que cesen al señor unzalu porque las cosas no se dicen se hacen y porque

uno de diciembre de dos mil dieciséis una noticia en el deia ortuzar reclama el fin de los recursos contra leyes vascas a rajoy antes de negociar las cuentas

rajoy ofrece retirar recursos contra euskadi a cambio del apoyo del pnv veintitres de diciembre de dos mil dieciséis una resolución de la comisión bilateral de cooperación

en el seno de esta comisión para analizar la ley doce barra dos mil dieciséis tres de mayo de dos mil diecisiete cierran el acuerdo presupuestario y de ahí a dos días el consejo de ministros acuerda interponer recurso de inconstitucionalidad contra esta ley veinte de mayo

treinta y uno de mayo se aprueban los presupuestos diez de octubre el tribunal constitucional recientemente confirma la suspensión

cuál ha sido la gestión suya en calidad de consejero de autogobierno ante la comisión bilateral de cooperación y en qué momento usted da por perdida esta ley eskerrik asko

zuk hartu duzun jarrera da nolabait espektadore batena dijo usted hace una semana o hace unos días que esto era una mala noticia lo cual suena algo fortuito algo accidental son cosas que pasan

qué pena son cosas que pasan era muy majo tenía buena salud pero es que a esta ley no le ha caído una teja no es algo fortuito no es algo accidental un imprevisto es un fracaso yo creo de la política de usted que debía de haberlo atajado que debía de haberlo conocido y además

esto cómo se gestiona desde esa comisión bilateral de cooperación que desde mi punto de vista no tiene nada

es unilateralidad y es imposición pura discrecionalidad ustedes hablan de la vía del pacto el lehendakari ha hablado de esto vehementemente en el primer punto y en las relaciones del gobierno con las relaciones o las relaciones con el gobierno español pero ellos entienden no la vía de pacto entienden la vía de facto es decir

haré lo que me venga en gana y con esta ley es lo que han demostrado

y qué víctimas podemos no reconocer y a usted le demando saber cuál es la alternativa eskerrik asko

que esto está sucediendo no solo en contra de la ética sino en contra de la ley y que para que esto suceda son necesarias una serie de colaboraciones o dejaciones

porque las decisiones están sometidas a la ley franquista de secretos oficiales

no lo que hay en los contenedores pueden ser bombas lanza granadas o salchichones de zamora hay muchas cosas que no sabemos pero algunas sí sabemos y lo sabemos

no por el gobierno vasco sabemos porque hay gente atenta que una vez al mes

la última carga esta misma semana sabemos gracias a los informes del ministerio de defensa y el informe armas sin control es un gran cliente de armas seiscientos cincuenta millónes de euros desde que empezaron los bombardeos en yemen y sabemos

dónde se fabrica parte de este armamento a finales de agosto en barcelona

esta imagen dio la vuelta al mundo se acusaba a los borbones de traficar con armas para contrarrestar esto abc

de fabricar esas armas con gráficos y todo pero

había un problema porque resulta que la categoría de armas municiones y partes y accesorios

acusándolos de complicidad pero resulta que sin mencionarlo resulta que el cincuenta por ciento casi de ese material

que va también hacia arabia y muchos otros países de cuestionable destino pero eso no interesaba destacarlo ahora somos los buenos vascos segunda pregunta qué hace el gobierno vasco para seguir la pista a las armas made in basque country más cosas

qué dice la ley algunos ejemplos el tratado de comercio de armas españa es firmante tiene una regla de oro el principio de no autorizar armas

que es vinculante en el derecho internacional la posición del consejo de europa vinculante también para españa

y no permite exportar en los siguientes supuestos cuando existan indicios racionales de que el material

o con fines de represión interna o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales veamos si esto se cumple una comparativa del código penal del estado islámico y arabia saudí son casi idénticas diré unos pocos datos dos mil dieciséis arabia ejecutó

a ciento cincuenta y siete personas los delitos adulterio traición

delitos de drogas hechicería etcétera etcétera etcétera esto es represión interna

según la consultora ares en yemen se ha confirmado la presencia de mucho mucho armamento español entre otros

y se está estudiando la presencia de bombas de aviación proyectiles de artillería y de carros de combate morteros etcétera etcétera

que si se tuviese conocimiento existiese riesgo de uso indebido el gobierno aplicaría el artículo ocho de la ley es decir nos portaría ese país

haya llegado a manos de la facción rebelde o sea el gobierno español no tiene constancia de lo que sale en vídeos y fotos de todo el mundo o más bien

sobre la dignidad del ser humano que también pide la ley y la legislación española dice

se tendrán en cuenta los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de naciones unidas etcétera pues bien un informe de la onu de dos mil dieciséis constató la comisión de crímenes de guerra por parte de arabia saudí en concreto ciento dieciséis ataque aéreos contra población civil en yemen

denunciando que arabia está provocando deliberadamente una hambruna mortal entre los civiles yemeníes

de una manera amplia y sistemática incluidas escuelas y hospitales y los ataques constituyen según el informe violaciones contra el derecho internacional y crímenes contra la humanidad

o la estabilidad regional a día de hoy van ochocientos bombardeos evidentemente los bombardeos esto esto les parece que es suficiente para ser considerado perturbador

desestabilizar la zona la región a mí sí

presentó el informe anual sobre niños y conflictos armados el texto afirmaba que la campaña militar que encabeza arabia saudí es responsable

incumpliendo la convención de los derechos del niños y siendo directamente crimen de guerra y según el informe de mayo de este año de la oficina de coordinación para asuntos humanitarios de naciones unidas diecinueve millónes de yemeníes carecen de acceso a comida mientras bombas y misiles siguen cayendo sobre la devastada estructura del país

de mayo y siento por la crudeza también es esta foto

se llama yalila yalila murió el mismo mayo porque arabia saudí

a toda la población del yemen otra pregunta

comparte conmigo que estos son más escandalosamente mucho más que indicios racionales de incumplimiento de derechos humanos y hago más preguntas ve usted indicios de crímenes de guerra de violación de derechos humanos de desestabilización de la región

es cínico y está fuera de la ley y que nos arrastra a todos por este precipicio y un aviso de amnistía internacional la autorización de la transferencia de armas incumpliendo las obligaciones como regla de oro de no autorizar armas para cometer atrocidades no solo viola el tratado de comercio de armas

o asistir a la comisión de un hecho internacionalmente ilícito y las personas que participen a sabiendas como cómplices podrían ser procesadas con arreglo al derecho penal internacional pues bien ya estamos a sabiendas estamos hablando de algo muy serio

qué va a hacer el gobierno vasco para garantizar que el comercio del puerto de bilbao

tenía razón señora tapia no podemos mirar solamente al último eslabón al puerto de donde salen las armas partiendo de lo que pasa en el puerto tenemos que elevar la mirada

y coercitivo y usted me lo reconocerá ahora y porque me dirá que no puede detener los envíos

con crudeza mirando atada la cadena y no solo al último eslabón la sensación de que hasta ahora el gobierno vasco no solo este todos los anteriores también se han preocupado mucho más de que la industria armamentística vasca tuviera su porción de tarta que en vigilar lo que pasaba con esas armas

de dinero público de operaciones de lavado de imagen social de sector se ha hecho y se ha hecho

que haya que seguir haciéndolo yo recuerdo aquí que bh orbea famosas por sus bicicletas fueron en su origen

nos reconvertimos o aplaudimos que haya guerras para que suba la producción o hay que explicar en esta cámara que para que le vaya bien a la industria armamentística hay que usarlas

si usted me dice que la internalización empresarial vasca se ha hecho acorde con los derechos humanos yo le digo que no está funcionando por lo menos

se han dado diversos pasos a nivel internacional y es evidente que aunque los organismos de control internacional y de los estados son importantes

y no son suficientes para evitar además la venta directa a esos países o de forma indirecta que se transfieran armas a través de otros países en los que teóricamente

muchas armas y municiones en esos países a los que teóricamente no había que haber enviado armas

en la asamblea general de la onu el tratado

este tratado ha sido firmado por el estado español y establece una serie de normas básicas normas a cumplir en comercio internacionales de armas dónde está el problema evidentemente como usted decía en el trabajo posterior de garantizar que ese tratado se está cumpliendo que se está cumpliendo adecuadamente y que se garantice de manera estricta que se adopten todas las medidas necesarias

en esta medida y no solo en establecimiento de normas reglamentos y autorizaciones

sino que ese evite el que esas armas puedan ser transferidas de forma indirecta a esos países en los que sí se están vulnerando los derechos humanos nos consta

este tratado y sin embargo se están produciendo todas esas imágenes y muchas otras

en muchos lugares tales como arabia saudí pero no es el único lugar en el que se están produciendo cuando arabia saudí ataca yemen pero no es el único lugar tenemos que trabajar porque que eso sea una realidad y usted decía tal como

tenemos que analizar todos los eslabones de la cadena y no quedarnos en el último

también transitan por nuestros ferrocarriles por tanto esos son los últimos eslabones pero cómo se trabaja y también le quería

porque cuando estamos hablando de venta a determinados países de situaciones complejas desde el punto de vista de derechos humanos por calificarlas de una forma suave hay dos elementos que hay que considerar uno son las armas concretamente

otra determinada cantidad de elementos de productos y de maquinaria que se está exportando que puede ser susceptible de ser considerada de doble uso como usted sabe

y ahí es donde tenemos que incidir y tenemos que trabajar como comunidad autónoma como euskadi tenemos

pero sin embargo sí es cierto que creo que realmente donde hay que trabajar es

y que realmente seamos capaces de establecer y de analizar dónde se están produciendo los problemas

en la venta directa como en esa venta indirecta y en ese traslado de armas y de otros elementos desde países donde teóricamente se podrían trasladar se trata de autorizaciones y licencias que tiene que dar el estado español donde no tenemos ninguna competencia y tal como dice el presidente de autoridad portuaria y usted hacía referencia a ellos donde la autoridad portuaria

no conoce qué es lo que se está qué es lo que esta transitando por el puerto sin embargo creo que esta cámara sí puede adoptar y yo creo que lo ha hecho

resoluciones y ser exigente con el estado español que es quien da

para todo este tipo de armamento y no armamento a países en conflicto eskerrik asko

ezer funtzionatzen me dice usted que el problema está en el trabajo posterior

el problema está en el trabajo anterior es decir qué se promociona y qué se fabrica tiene mucho que ver con después lo que con lo que después pasa porque claro no es lo mismo enviar pistolas para la policía de

que enviar armamento pesado a arabia saudí y se está haciendo todo no yo lo que veo es que el gobierno vasco hablo del gobierno vasco sobre todo lo que ha hecho es encogerse de hombros diciendo nosotros aquí poco podemos hacer

ningún pronunciamiento público que yo creo que es algo que ayuda mucho no se ha presentado quejas formales que yo sepa o exigencias o medidas para controlar todo este desaguisado no se ha mostrado tampoco solidaridad no ya el gobierno sino

para el bombero ina robles que por conciencia completamente justificada no participó en un operativo de cargas de bombas para arabia como grupo

de armas a arabia saudí sorprendentemente después de todo esto y lo que sí se ha hecho y lo que a mí sí me parece grave y quiero dejar claro es poner la maquina diplomática y de imagen vasca en favor de los negocios

de la ley la ley vasca de dos mil siete carta de justicia y solidaridad con los países empobrecidos en la que se dice textualmente en su artículo tres que

el gobierno vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción comercialización y financiación de armas yo creo que el artículo es claro la ley es clara pues bien en la legislatura anterior usted como responsable de industria el trece de junio de dos mil catorce asiste junto a urkullu

y el país que tengo aquí el recorte titula

como ejemplo no de empresa sino como ejemplo de la política económica del gobierno vasco y destaca textualmente

turbopropulsor de euskadi sin embargo veinticinco años antes nació por y para la industria militar concretamente para construir

eurofighter y por si no quedará clara la vocación militar el veintitrés de noviembre de dos mil quince tuvo lugar en una planta de itp el acto de inauguración del monumento al caza mirage f uno que fue cedido a la compañía por el ejercito de aire ese día ignacio mataix director general de itp agradeció al gema

de la aeronave para el monumento con el que se quiere conmemorar el hermanamiento histórico existente

noviembre de dos mil quince por cierto ya habían empezado los bombardeos sobre yemen

más de ochocientos veces la población del yemen con el eurofighter el eurofighter tifón quién hace quién participa en el eurofighter tifón itp sener entre otras y qué carga el eurofighter aquí

y quién los hace sener y aernnova entre otros

al más reciente el mes pasado cincuenta años de la asociación armera

discurso del lehendakari a la asociación armera sois referentes en la apuesta por la internacionalización y la innovación

nuestra misión es seguir colaborando trabajando juntos impulsar la competitividad etcétera etcétera con toda la plana mayor del gobierno y el parlamento

y repito el gobierno vasco no colaborará de ninguna forma

a la producción comercialización y financiación de armas dónde queda el principio de

entonces en qué quedamos en qué quedamos no se pueden parar los envíos de armas porque no lo permite la ley

debemos parar los envíos de armas y la promoción

porque nos lo exige la ley el sentido común y la ética eskerrik asko otero jauna tapia andrea zurea da hitza

beste hainbat proiektu dituztelako porque además son capaces de articular

ejemplo y no nos avergüenza y no nos debe avergonzar como país decirlo

y de generación de riqueza porque lo hacen bien pero no estábamos hablando de arabia saudí usted quería llegar a otro lugar usted quería llegar a otro lugar diferente y

dónde hemos estado efectivamente pero no porque nos saquen todos los días un montón de fotografías nos vamos a avergonzar de que estamos defendiendo el tejido económico de este país no eso es lo que creemos que tenemos que hacer porque otras veces además nos lo exigen y entonces a veces sí a veces no depende cuando me apetece sí o no

para hacerlo bien sí es verdad analizando y vuelvo a donde estábamos si tenemos algún tipo de actuación que hacer en las licencias en el trabajo con la comercialización de las armas no le consta al gobierno vasco no es competencia del gobierno vasco hacerlo pero sí es competencia nuestra y en esta cámara en esta cámara ha habido pronunciamientos

hace las correspondientes o toma las correspondientes decisiones y actuaciones donde las tiene que tomar pero no es competencia nuestra pero si estamos hablando de aquello hablamos de aquello y no me lo mezcle con lo de la segunda intervención que nada tiene que ver nada tiene que ver con lo que usted me estaba diciendo

el tejido económico de este país va a seguir siendo defendido por este gobierno sí porque genera empleo y riqueza también y lo va a tener que seguir haciendo en todas y cada una de las formas por supuesto siempre garantizando los derechos humanos siempre garantizando el bienestar de las personas no tenga usted la menor duda y en el plan de internacionalización porque también hacía referencia a eso que vendrá a esta cámara también para su conocimiento verá usted que también tiene un aspecto muy concreto
que se refiere a ello pero no mezclemos temas porque si es una cosa es una cosa y es si es otra es otra eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

aparecía en los medios de comunicación una noticia que hacía referencia a la posible transferencia de dos líneas

al gobierno vasco de cara al ejercicio dos mil dieciocho por otra parte tenemos que euskotren tiene un negocio de transporte de mercancías que a día de hoy no es rentable entonces mi pregunta es cómo cree usted si cree que esa transferencia de líneas puede mejorar la rentabilidad de negocio de euskotren y en caso

como decía señor becerra con fecha trece de diciembre de dos mil trece ya el departamento de medioambiente y política territorial del gobierno vasco detectó

el estado había dos líneas que correspondían a la comunidad autónoma

y efectivamente esas dos líneas son susceptibles y se han de transferir a la comunidad autónoma y al gobierno vasco son las líneas concretamente de aritz basurto y la de

lutxana en este caso estas dos líneas sí hay que señalar que no formaban ya parte de

sino que ya formaban parte de adif desde el año dos mil catorce y eso significa unas ciertas dificultades en el momento de trabajar con ellas puesto que ya son parte de la red de interés general en cualquier caso estas dos líneas han de ser transferidas al gobierno vasco pero todavía no han sido transferidas puesto que la comisión mixta de transferencias no se ha reunido

única y exclusivamente tráfico de mercancías como usted bien dice y las mercancías que transitan por esas líneas comienzan o terminan fuera de la comunidad autónoma

deberá tener una serie de licencias y una serie de actuaciones como usted bien conoce para poder utilizadas no solo en el tramo de la comunidad autónoma sino saliendo de la misma

también le comento que en estos momentos a día de hoy la licencia de empresa ferroviaria para viajeros y mercancías ha sido renovada y se ha obtenido la renovación en veintiuno de junio de dos mil diecisiete luego esa la tenemos el certificado de seguridad

el certificado de seguridad de viajeros ha sido solicitado el ocho de julio de dos mil dieciséis y está pendiente de resolución y las homologaciones de material rodante de euskotren

y también estamos en proceso de homologación por tanto estamos preparando todo para cuando tengamos la transferencia podamos utilizarla y efectivamente

dos mil siete el gobierno vasco aprobó el plan estratégico veintiuno en el cual preveía incrementar el transporte de mercancías multiplicarlo por cuatro respecto al que tenía en dos mil siete

y a día de hoy es de un tercio del que había en dos mil siete aun así el plan estratégico preveía una inversión de setenta y dos millónes de euros que se

de las doce locomotoras una se alquiló siete están paradas

a día de hoy el servicio eusko kargo entre dos mil diez y dos mil dieciséis pierde

y en dos mil catorce por poner solo un ejemplo sus ingresos fueron de novecientos sesenta y seis euros recientemente en dos mil catorce el gobierno en el que usted está ha aprobado al estrategia basque country logistics que

digamos de euskotren y plantea una serie de plataformas logísticas la construcción de una serie de plataformas logísticas como arasur el

incluso son enormemente deficitarias yo le he preguntado por la cuestión de la transferencia de las líneas porque es un factor que podría ayudar a la rentabilidad del negocio conozco perfectamente que efectivamente euskotren está consiguiendo todos los certificados la cuestión es

no basta con construir plataformas logísticas que luego vayan a estar vacías no basta con adquirir locomotoras y vagones que se vayan a quedar parados a día de hoy

dos clientes y el principal que tenía en dos mil siete se le fue porque los vagones que se compraron

llevar la mercancía tapada que era lo que necesitaba ese cliente entonces no es exclusivamente una cuestión de tener los certificados sino de si el negocio de transporte de mercancías de euskotren que reconozco que es necesario porque hay que pasar las mercancías de la carretera al ferrocarril es en sí rentable y cómo se puede hacer rentable y la pregunta que habría que hacerse es si esa transferencia

y si no es esa transferencia de líneas qué es lo que puede hacer que el negocio de mercancías de euskotren sea rentable para que no tenga que cerrarse porque a día de hoy

es un agujero pequeñito de los más pequeñitos no es comparable con el que van a tener ustedes con el tren de alta velocidad pero es un agujerito más de los que tienen dentro de las cuentas del gobierno nada más

kargo pierde dinero es cierto es cierto los tráficos de mercancías son cada vez menores en este momento pero no solo en el caso

es el único lugar donde el tráfico de mercancías por ferrocarril se reduce y algo tenemos que hacer pero sí le voy a decir que

porque aún en el caso de que no se transfieran en breve estas líneas podríamos operarlas a través de euskotren

y podamos introducir más tráfico en estos momentos hay clientes que nos están demandando poder

y tenemos que trabajar pero no es solo tener un cliente y poder llevar el tráfico de mercancías por ferrocarril

en muchas de sus zonas en vía única eso también introduce unas restricciones muy importantes y nos obliga a tener que

en muchos casos va unido también a la mejora de la propia red que también estamos abocados a trabajarla para viajeros pero que incidirá en la mejora de las mercancías y no me escapo el tren de alta velocidad en este momento no es competencia nuestra aunque nos gustaría poderlo gestionar

anderea gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera javier ruiz de arbulo cerio euskal

gracias señora presidenta señoras consejeras consejeros señorías buenos días a todos

más intereses y más gastos fue la cantidad señora tapia a la que tuvo que hacer frente el parque tecnológico de álava para tapar

el sueño automovilístico de la era ibarretxe y todo gracias a las espurias actuaciones del señor sánchez alegría entonces alto cargo del gobierno vasco

en la comisión de investigación en este parlamento como también sabemos que quien es responsable penal de un procedimiento es el responsable penal de un delito lo es también civilmente del daño causado

y es que un juzgado de la capital alavesa acaba de terminar la instrucción por esos hechos en concreto y ha investigado tanto al señor sánchez alegría como a los

de álava todos ellos cargos del partido nacionalista vasco y la mayoría de ellos además investigados por otras tramas y corruptelas evidentemente no le pregunto a usted porque tenga nada que ver

la recuperación en lo posible del daño producido al erario público y lo que nos gustaría saber es

qué opinión tiene al respecto y si efectivamente si no lo ha hecho si lo va a hacer o lo va a dejar todo en manos del ministerio público que es el que lleva la investigación y la acusación en este momento y como sé que usted se prepara muy bien los temas igual seguro que nos puede facilitar

empezar a referirnos a la cuestión a la que usted hacía referencia es necesario

para poder responder de una forma creo que más concreta la pregunta que me estaba haciendo

de álava recuperó una parcela urbanística y adquirió además un edificio y un conjunto de elementos un conjunto de instalaciones que había allí y el precio concreto fueron dieciocho millónes novecientos treinta y siete mil quinientos ochenta y tres euros

las ventas se produjeron con margen positivo que seguro que le preocupa a usted y

pero además si nos acogemos a cifras porque usted estaba hablando además de un posible resarcimiento del erario público cualquiera de estas cifras que le estoy dando está por debajo del valor que en estos momentos la sociedad

por una tasación realizada a uno de enero de dos mil diecisiete a petición de los auditores de la propia sociedad y la tasación dice que estos activos tiene un valor de veintitrés millónes ciento ochenta y siete mil setecientos euros es decir

uno porque no se ha vendido en pérdidas y segundo porque además la valoración es positiva beste alde batetik gainera aipatzen zenidan ea

quebranto económico alguno para el erario público porque tenemos unos activos muy importantes que tasados están por encima del valor pero lo que no nos ha dicho usted es que esos activos no sirven absolutamente para nada que nadie está interesado en ellos

por mucho que inmobiliariamente estén tasados en un valor de veintitantos millónes de euros

un activo que no necesita un activo que no tenía intención de quedarse con él sino que tuvo que hacer el esfuerzo puesto que un alto cargo de ese gobierno

quebranto económico porque me he tenido que quedar con un inmueble que yo no quería la situación del gobierno y que no me sirve para nada entendemos que sí existe quebranto
económico y eso es lo que me gustaría que me aclarara gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna tapia andrea zurea da hitza

adecuada y en el momento adecuado quebranto se produce cuando uno vende unos activos por debajo de su valor o si están tasados incluso por debajo de su valor y no se ha producido ni lo uno ni lo otro

sin ningún tipo de justificación sin ningún tipo de valoración es decir quién dice que esos activos técnicamente no sirven a nadie quién lo ha dicho acaso no hay personas interesadas acaso no hay empresas interesadas sí las hay otra cosa es que esos activos tiene un valor muy elevado para

determinadas empresas determinados interesados que los puedan adquirir en estos momentos pero

y quiero dejarlo muy claro la valoración de que esos elementos no sirven para nada es exclusivamente suya no ateniéndose a ningún informe relevante ni de rigor dos que alguien haya hecho trampas también es una valoración suya que desde luego creo que no ha lugar aquí si hay un procedimiento abierto

decidirse pero desde luego usted no es juez ni emite sentencias en este caso y el quebranto no se ha producido en ningún caso porque no se da ninguna de las dos circunstancias

son los que existen y desde luego están suficientemente probados quebranto no hay y si el juez dice algo diferente lo valoraremos pero usted no es el juez y no es quien dicta la sentencia

decía que las políticas de familias son una prioridad para el grupo popular para el partido popular esto ya se ha plasmado

legislaturas y es algo que además es por absoluta convicción para nosotros

institución fundamental de la sociedad que la vertebra y además realiza una función insustituible en el desarrollo personal del individuo en su propia socialización

quiero recordar la primera interpelación que presentamos en esta cámara fue en relación a las políticas de familia que motivó una

a continuación en la que posibilitamos un acuerdo que nos parecía claramente insuficiente en relación a los objetivos que entendemos que este ejecutivo el ejecutivo de las personas que tanto nos reitera el señor urkullu tenía que tener en relación con la

un acuerdo porque algo es algo por lo menos en materia de políticas

al analizar los distintos aspectos que se llegaron al acuerdo en ese texto

hemos considerado oportuno volver a incidir en este aspecto y saber ya de una vez por todas y dado que ya ha transcurrido un año de legislatura y puesto que si queremos poner en marcha

para la familia y para la infancia en la que se va englobar el cuarto plan de familia que tiene un retraso

acababa su vigencia en el año dos mil quince queremos

tiene una apuesta decidida en las políticas de familia y por otra parte si aquí también

la consejera en la interpelación formulada de que estaban en un proceso de reflexión también digo que en la anterior legislatura los dos consejeros que tuvieron las responsabilidades en esta materia también nos dijeron

proceso de reflexión que parece que culminó en un borrador de estrategia pero no sé si

no se proporcionó al actual responsable de este departamento como decía nuestra preocupación

iniciativas sino también en hechos concretos recordará señora consejera que en la negociación presupuestaria incrementamos la partida inicial para las ayudas económicas con hijos e hijas en tres millónes y medio

y también conseguimos recoger en el acuerdo

una disposición un punto muy exacto en relación a la eliminación progresiva del recorte del siete por ciento que ustedes tanto criticaron al gobierno de patxi lópez sí que es cierto que nosotros no estábamos en el gobierno señora consejera apoyamos a ese gobierno también es cierto que las circunstancias eran muy distintas a la

hay índices claros de la recuperación económica y en donde además ustedes también

más dinero dado que también los ingresos han ido bastante mejor que en ejercicios anteriores por lo tanto esperemos que esa previsión contenida en el acuerdo presupuestarios de ir eliminando progresivamente ese recorte se materialice como digo ese recorte que ustedes criticaron al gobierno de

lo han mantenido en este primer ejercicio

espero que sea una prioridad compartida y sobre todo por los datos que tenemos tenemos una de las tasas de natalidad más baja

decía en la contestación a la interpelación que en el dos mil quince se redujo en un dos coma ocho por ciento en el dos mil dieciséis un dos coma uno por ciento y que

también en la evaluación del tercer plan de familia que por fin ha llegado con retraso porque también lo pedimos

y también se alerta de la disminución o de la caída de los nacimientos un veintidós por ciento

datos alarmantes y que le tienen que llevar a este gobierno sin ninguna duda a tomar

y nombrar que no me voy a detener mucho en ello obviamente por falta de tiempo el informe del ararteko al que también cité en

políticas de apoyo a las familias de euskadi sus análisis y propuestas eta txosten honetan ere gomendioak eta konklusio zehatzak ematen ziren eta uste dut

la edad de emancipación es una de las más retrasas que en otros lugares

datos más desde luego nosotros consideramos que hay que

en las ayudas económicas tanto por nacimiento por conciliación en las políticas de conciliación en la educación en el ámbito del empleo en la conciliación laboral

mayores inversiones públicas conciliación y cómo no también apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad y como se ha demostrado y queda también patente en el informe de evaluación

en medidas concretas de apoyo a las familias con cuantías económicas concretas

repercuten directamente en la disminución de la pobreza infantil y de la situación de las personas más vulnerables

con objetos y finalidades muy concretas también los planes interinstitucionales y cómo no las disposiciones reglamentarias de desarrollo

pero ya digo que se nos hablaba la legislatura anterior ya en el debate de política general del último que tuvimos la pasada legislatura en el año dos mil quince el propio lehendakari

es que llevamos dos años es el mismo lehendakari y no hemos visto esa estrategia de familia que como además he señalado es fundamental

en el dos mil quince como usted muy bien sabe señora consejera y por lo tanto en dos mil dieciséis se supone

de familia el cuarto plan de familia por otra parte en el programa de gobierno

las ayudas a familias con hijos e hijas extendiendo progresivamente de dos a tres años las ayudas económicas por el segundo hijo

puntos del acuerdo que han motivado esta interpelación efectivamente pusimos al gobierno deberes para que llegara la evaluación del tercer plan interinstitucional ha llegado pero obviamente bastante tarde teniendo en cuenta que el tercer plan acabó su vigencia en dos mil quince ya siento que igual se aburre señora consejera pero esta es la realidad pura y dura

también solicitábamos que se remitiera esa estrategia a la mayor brevedad posible y es que no la tenemos y este acuerdo como le digo es de nueve de marzo y desde luego el punto

insuficiente por eso señora consejera le preguntamos claramente y en relación también a ese proceso de reflexión que usted inició cuándo vamos a tener esas estrategias señora consejera que hay un borrador cuándo lo vamos a tener y cuando vamos a tener ese cuarto plan de familia

esos aspectos concretos porque desde luego vemos que por ahora no vemos esa

de su gobierno y ya digo que es absolutamente preocupante este aspecto cuando ha sido un gobierno que se ha erigido en el gobierno de las personas no solo esta legislatura sino también en la anterior legislatura

ya el gobierno vasco en el marco de las competencias que tiene atribuidas da un apoyo decidido a las políticas de familia y se lo voy a intentar demostrar

en el departamento de empleo y políticas sociales junto con el resto del gobierno desarrollamos políticas dirigidas a favorecer y apoyar a las familias y el desarrollo pleno de sus miembros

se desarrolla la semana de la familia y en diversos actos públicos tanto en vitoria gasteiz bilbao y mañana en donosti destacamos la importancia que tiene la familia como pilar de nuestra sociedad

que nos vertebra y que se adecúa permanentemente a los cambios y evolución que la propia sociedad vive además se trata de una institución muy bien valorada en nuestra sociedad

en la estimación de nuestros jóvenes siendo el aspecto de la vida

y en esta cámara somos conscientes de la evolución y cambios que han vivido las estructuras familiares durante las últimas décadas la sociedad exige a los distintos miembros de las familias una permanente adecuación a las nuevas formas de vida lo que nos ha llevado

demográfico y sociológico de euskadi que por cierto es similar al de nuestro entorno y afectado por la crisis económica de los últimos años y es evidente

está estrechamente relacionada o ligada al ciclo económico

portavoces y estudios especializados de la unión coinciden en explicar que la causa fundamental de la baja fecundidad está relacionada con las condiciones que favorecen u obstaculizan el nacimiento de un segundo hijo o hija

a las familias vascas les gustaría tener al menos dos hijas o hijos

de más servicios para el cuidado un aspecto fundamental para conseguir este objetivo es que el estado amplié y actualice las bajas de maternidad y paternidad en la actualidad está establecido en dieciséis semanas para las mujeres y cuatro para los hombres muy lejos de los países avanzados de europa por ejemplo suecia

a repartir entre los dos progenitores es evidente que todo lo que afecta a la vida de las personas de las familias y a sus perspectivas de futuro

teniendo todo esto en cuenta en euskadi desarrollamos una serie de políticas basadas en la ley de apoyo a las familias

tenemos en cuenta el cambio del contexto social y económico y las necesidades de las familias actuales es por ello

una estrategia que parte de la necesidad de articular un paquete coordinado de políticas y que estará aprobada para el primer trimestre del año dos mil dieciocho mientras tanto trabajamos para que los jóvenes y las familias puedan incidir

y también para que se consiga una mayor protección a las familias con menores

se contempla esta situación también hemos planteado la modificación del decreto regulador de las ayudas económicas para aumentar la protección de las familias además de apoyar económicamente a las familias también estamos reforzando otros servicios y programas de acompañamiento

asimismo en la mesa de diálogo social se ha creado un grupo de trabajo que participa en nuestra estrategia que junto con las empresas

están analizando con nosotros la promoción de la conciliación laboral y familiar la principal característica de este nuevo paradigma es el cambio de orientación de unas políticas orientadas a la reparación a otras políticas orientadas a la preparación a partir de la consideración de las políticas familiares educativa y de igualdad de género

la satisfacción por la iniciativa que estamos llevando adelante ello supone un elemento clave para el desarrollo social y económico desde este punto de vista y desde este punto de partida este enfoque pone su atención

en la generación de las condiciones para un mayor nivel de igualdad de oportunidades y movilidad social en facilitar los procesos de emancipación y transición de la edad adulta en apoyar a las familias con hijos e hijas y en facilitar el acceso de las mujeres al empleo de calidad y remunerado

formarán junto con otras perspectivas las orientaciones que recogemos en la nueva estrategia el compromiso que tiene este gobierno con las familias es firme

el gasto público que hacen las diferentes instituciones en euskadi ha pasado del cero coma veintidós por ciento del pib en mil novecientos noventa y cinco

euskadi con sesenta y tres coma cinco millónes de euros es la comunidad del estado

es la única comunidad autónoma que concede ayudar por nacimiento y adopción con criterios de universalidad y de derecho subjetivo la única isidro elezgarai presidente del comité vasco de unicef

podrá crecer con un nivel de bienestar infantil superior a la media europea

el principal logro de los últimos años ha sido mantener el nivel de bienestar en plena crisis sin producir recortes y ello ha supuesto un paso hacia delante no es solo una cuestión económica señora garrido insisto la responsabilidad sobre la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad es de vital importancia para un cambio social en la gestión de la natalidad y esa recae en la administración general del estado

y en los diez primeros meses de esta actividad de este gobierno hemos puesto en marcha diferentes iniciativas una experiencia piloto para la conciliación en tres empresas hemos aumentado los recursos para agilizar las tramitaciones de ayuda reduciendo en dos meses el periodo de tramitación de las mismas hemos creado en la mesa de diálogo social un grupo de trabajo para trabajar en la estrategia de familia

estamos finalizando nuestra estrategia de familia e infancia que se aprobará en el primer trimestre de dos mil dieciocho proponemos un pacto por la familia e infancia junto con los ayuntamientos eudel diputaciones forales y el resto de entidades y un pacto que esperemos alcanzar en los próximos meses nuestro esfuerzo está dirigido a evitar que se transmitan las desventajas entre generaciones con el convencimiento de que representa una inversión crucial para el futuro de europa y de euskadi y supone un gran beneficio a largo plazo para la infancia la economía y la sociedad en su conjunto

al aumentar la productividad y garantizar un crecimiento sostenible para nosotros para todo el gobierno vasco y para la sociedad en general la familia constituye uno de los nuestros principales valores sociales que debemos proteger

y al desarrollo pleno de sus miembros se trata de un objetivo que requiere un gran pacto social en el que estamos trabajando y para el que se precisa un apoyo general la estrategia de familia y de infancia estará aprobada a finales del primer trimestre de dos mil dieciocho

de familia en el que se concretarán las iniciativas

una política familiar que nos permita alcanzar los objetivos que tanto ustedes como nosotros pretendemos eskerrik asko

esa política decidida por la que este grupo preguntaba no la veo por ningún lado la verdad es que me ha decepcionado y me deja preocupada porque en el acuerdo de nueve de marzo del año pasado que ustedes suscribieron señalaba

se traería a esta cámara a la mayor brevedad posible el lehendakari mismo lehendakari el señor urkullu ya hablaba la pasada legislatura en el pleno de política general de dos mil quince que enseguida

por lo tanto yo creo que en esta materia llevan ustedes un retraso

a las políticas de familia que se tienen que poner en marcha en esta comunidad autónoma

vemos una clara apatía en este ámbito

retraso en el marco que da soporte a las políticas de familia la estrategia pero si ustedes ya tenían un borrador la pasada legislatura si lo hizo referencia el señor toña en varias ocasiones el propio lehendakari en dos mil quince en el pleno de política general que ya se lo he dicho unas cuantas veces en estas intervenciones nos hablaba

en pocos meses tendríamos una estrategia de familia para la infancia hombre sí que es cierto que además

claro se pensaban hacer las elecciones en junio pero luego coincidieron con las generales el propio lehendakari también hablaba de una estrategia de familia con una inversión plurianual de doscientos millónes de euros

porque si usted me dice que no llega la estrategia hasta el año que viene entiendo que como en función de esa estrategia van a derivar líneas de actuaciones

eso no va a tener una plasmación o las medidas

en los presupuestos de dos mil dieciocho señora consejera por lo cual la promesa del lehendakari pues claramente incumplida ya sabíamos que era una promesa electoralista pero lo hemos comprobado

con los hechos esperemos que ustedes que se jactan de ser leales y que cumplen los pactos

las cuantías de las ayudas a las familias y también visualicemos en los próximos presupuestos esa previsión en el pacto presupuestario

paulatinamente y progresivamente el recorte del siete por ciento ese recorte que ustedes tanto criticaron al gobierno de patxi lópez que hubo que hacerse por circunstancias absolutamente excepcionales pero que en momentos que está incrementándose la recaudación espero que ustedes

los cuatro años anteriores que tanto criticaron la anterior legislatura y que no quitaron ese recorte del siete por ciento le voy a decir por qué

primero porque ustedes también han incumplido las previsiones marcadas en el tercero plan de familia segundo porque ustedes

con la unión europea en el año dos mil veinte ustedes van con muchísimo retraso

el ochenta y ocho por ciento de las familias que tienen niños

de estar criándolos son favorables a aumentar las ayudas a la conciliación

ve un instrumento muy necesario y muy positivo el incremento de estas ayudas

que en signo contrario a lo que ustedes han hecho estos años y también viene en la propia evaluación del tercero plan de familia

ejecutadas ustedes tienen que recordar que en el primer año de la legislatura de urkullu también redujeron las ayudas a la conciliación a la mitad por lo tanto esas políticas no eran absolutamente prioritarias

no han disminuido en los años de recesión las ayudas a las familias las han incrementado del siete coma seis por ciento al ocho coma dos por ciento del periodo mil novecientos noventa y tres al dos mil cuatro por lo tanto señora consejera mucha decepción obviamente esta interpelación motivará
una nueva moción poniendo deberes a este gobierno eskerrik asko garrido anderea

siento decepcionarla señora garrido no era mi intención y desde luego creo que

así lo estamos haciendo con un seguimiento que hacemos personal usted y yo en relación a las ayudas y a los compromisos que hemos adoptado y este gobierno

tiene a bien siempre cumplir con los pactos y con las palabras que da si tiene algún retraso en la estrategia que se está realizando no es porque únicamente se achaca hablar del gobierno sino porque también las propias asociaciones y los colectivos están trabajando en la misma solicitaron y solicitan una ampliación para poder realizar una estrategia que desde luego entendemos todos que es importante que hay que hacerla con rigor y que tenemos que contar con la colaboración de todos los agentes por eso también se ha creado ese grupo de trabajo dentro de lo que es la mesa de diálogo social y demás por tanto

lo que promueve es esa estrategia interinstitucional porque también se lo he dicho en ocasiones señora garrido

este problema en cuanto a la natalidad en cuanto a la familia en cuanto a la infancia no solamente lo va a resolver este gobierno somos conscientes usted también lo es y además esto en ocasiones lo hemos tratado y lo hemos hablado

diputaciones ayuntamientos sindicatos patronal asociaciones familias y en ese afán de alcanzar

es el que estamos inmersos y además de una forma importante

pero además de avanzar en aquellos objetivos que son de nuestra competencia

algo muy importante que tienen esos primeros años para el desarrollo futuro

niños verdad y es que el sistema estatal de permisos por maternidad y paternidad resulta claramente insuficiente y usted nunca ha dicho nada de lo que son los permisos de paternidad y maternidad estaría bien que también aparte de decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer le diga también a sus compañeros del gobierno central que pudieran tener a bien revisar mejorar

permisos de paternidad que sí que facilitarían de una forma evidente y real el que las mujeres y los padres pudiéramos tener los hijos que queremos es una parte que desde luego usted yo nunca le he oído decir nada en relación al gobierno central insisto también que uno de nuestros principales objetivos es el apoyo a las familias y apoyamos a las familias para transformar esa tendencia

una relación directa entre las ayudas económicas y las tasas de natalidad euskadi es la comunidad autónoma del estado que más invierte y es la que tiene la baja de natalidad más baja por tanto habrá que hacer algo diferente a simplemente dar unas ayudas esto ya se lo he comentado en ocasiones y en eso estamos y además es que somos los únicos que tenemos estas ayudas con carácter universal y como derecho subjetivo además de recursos económicos las personas también necesitan para hacer su realidad su deseo de tener descendencia otra serie de servicios en el ámbito educativo

en la definición de la estrategia es fundamental el carácter multidimensional de la misma ya que esto es un proyecto de país que no solo atañe al gobierno sino que atañe a toda la sociedad en su conjunto

de los plazos de tramitación de las ayudas estamos reduciéndolo en dos meses

el gobierno vasco en el marco de sus competencias tiene atribuidas dar un mayor apoyo

pero es evidente que la familia constituye uno de nuestros principales valores y que no podemos hacer en función de las iniciativas que presentemos señora garrido los datos son bastante cabezones si se me permite la expresión en el ámbito de la conciliación en el presupuesto del año dos mil catorce había diecisiete millónes destinados a estos

en el presupuesto del quince subimos la cuantía a treinta y uno

es decir es verdad que tendremos que hacer un trabajo es verdad que tenemos muchas cosas por hacer pero es verdad también que solo con ayudas económicas no lo vamos a conseguir mila esker

una noticia en relación a un caso de estafa que se está investigando por el juzgado de instrucción de bilbao

estafas cometidas por centros de formación contra lanbide y al margen del procedimiento judicial correspondiente

sobre esta cuestión usted ha solicitado una comparecencia nosotros también donde le preguntaremos exhaustivamente sobre los controles existentes para estas acciones

de las personas desempleadas pero sí nos gustaría saber también a parte

de tratar este asunto en esa comparecencia específica porque hay voces

denuncias o han manifestado irregularidades en lanbide y queremos saber si usted

que se han procedido a realizar y en definitiva qué le parecen todas estas situaciones

de supuestos fraudes en la gestión de los cursos de formación eskerrik asko garrido andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

en el mismo momento en que un técnico de lanbide detectó estas circunstancias a comienzos de año

seguimiento del caso por tanto en el momento en que yo fui consciente de que se estaba produciendo algún tipo de situación desde luego que merecía

yo di la orden de que se llevara a cabo dicha investigación durante estos meses en lanbide y junto con la ertzaintza

y hemos colaborado activamente con la policía vasca desde que detectamos este caso dejando a un lado las interpretaciones informativas en los diferentes medios de comunicación cuya elaboración y contenido lógicamente no nos corresponden a nosotros y desde un primer momento lanbide realizó un detallado estudio y seguimiento del caso

irregularidades obedece a las revisiones efectuadas por lanbide sobre las acciones formativas subvencionadas

las acciones formativas se han llevado a cabo el alumnado de las mismas ha sido formado en las materias correspondientes y quienes cumplían

han recibido sus correspondientes títulos acreditativos y lanbide verifica el logro de los objetivos de todas las acciones formativas que subvenciona y se ajustan a las subvenciones

el importe de las mismas y recuperando el total en los que se considera que los objetivos definidos no se han alcanzado en ocasiones esto no es achacable a los centros la responsabilidad sino

se realiza una recuperación

de las subvenciones aportadas los datos objetivos nos hacen ver que son casos puntuales y aislados y para aclarar lo relacionado con esta cuestión nada más conocer por el medio de información o una vez que se publicó en un medio de información lo que nosotros ya teníamos detectado desde febrero solicité mi comparecencia en el parlamento
y será en esa comparecencia en la que dé todo tipo de detalles de cuáles son los procesos de control en cuanto a las subvenciones en los casos de la formación eskerrik asko

de a cuánto asciende el fraude total qué cantidad se ha recuperado de dónde partió la denuncia si de algún particular

hablaremos si hay algún control también qué tipos de controles hay sobre los cursos impartidos creo que esa comparecencia

para bastante porque es un tema también complejo y además sobre el que se pueden hacer muchas preguntas para efectivamente corroborar que existen los suficientes controles y que se realizan los controles pertinentes en relación a los cursos de formación

estamos hablando de una ingente cantidad de dinero público y además dinero público destinado a la

desempleados a nosotros por lo tanto noticias relacionadas con

nos preocupa y además nos preocupa en este caso que hemos conocido del que ya le digo

comparecencia porque parece ser por la información que también hemos podido recabar por parte de este grupo que no estamos hablando de un periodo de un solo año sino que estamos hablando

en el tiempo es decir cuando ya se producen actuaciones prolongadas en el tiempo es que fallan los controles clamorosamente ya le digo que hablaremos de forma exhaustiva sobre este asunto y desde luego allá donde no hay controles pues hay situaciones o es susceptible de que aparezcan situaciones

una pregunta bastante concreta señora consejera y además me gustaría

me contestara de forma exacta fehaciente y concisa y clara usted ha tenido constancia de situaciones irregulares

de reclamaciones concretas en relación a estas situaciones que se hayan podido realizar o conocimiento de irregularidades que se hayan denunciado correspondientes a otras épocas y finalmente le tengo que decir que

no sé ojalá sea un caso aislado señora consejera pero cuando vemos que son un caso importante que afecta a uno millón de euros de cantidades defraudadas de las que parece que solo se han recuperado trescientos mil euros pues no estamos hablando de un caso pequeño y tampoco
parece ser que sean casos aislados como usted está diciendo y al final se evidencia una vez más que la gestión de lanbide no es como debe ser eskerrik asko garrido andrea artolazabal andrea zurea da hitza

cuestión de responsabilidad lo que tenía que hacer primero es escuchar las explicaciones que desde el gobierno tenemos que realizar en esta y en todas las materias y luego dar su opinión

sigue las diferentes circunstancias que se pueden dar en sus servicios de formación y en otra serie de servicios tanto como la gestión del empleo la inclusión social nosotros detectamos

este caso la respuesta es que cuando yo conocí esta situación solicité más información en relación al caso y yo en este momento no tengo

circunstancias irregulares nosotros cuando conocimos el caso

la persona también con perfecto derecho también se ha personado en el juzgado

meridianamente claro señora garrido es que esta situación si se ha denunciado ha sido porque los controles que en este momento están

han sido eficaces que haya que mejorarlos seguro no me cabe duda en eso estamos en un plan de modernización de lanbide pero que lo que ha pasado ha sido porque detectamos nosotros en lanbide que se estaba produciendo esa circunstancia

egin duzue seiscientos millónes de euros fruto de las retenciones unilaterales del gobierno de españa durante años seiscientos millónes que tenían que haber estado aquí

años de esa cantidad le quedan unos cuatrocientos millónes aproximadamente para el gobierno vasco una cantidad desde mi humilde opinión nada desdeñable

demasiados años moviéndose en las estrecheces presupuestarias eta horregatik nire galdera sailburu jauna zertan

andrea legebiltzar kideok egun on denoi pinedo andrea soy consciente de que esta cuestión no es sencilla

la regularización se refiere al total de los flujos y discrepancias que se tenían en relación con la aplicación de la normativa del cupo vigente y no solo a las derivadas

desadostasun guztiei buruzkoa delako la comisión mixta de concierto de mayo

definitivos del periodo dos mil siete dos mil quince así como el provisional del año dieciséis y también las compensaciones definitivas correspondientes a esos años

trescientos sesenta y uno más o menos están aun disponibles para el conjunto de administraciones públicas como usted

más o menos la necesidad de regularización de las liquidaciones derivadas de los cupos afecta de distinta manera

de las competencias que ejerce cada una por ello

compensar a los territorios históricos con noventa y uno millónes de euros gobernuak

ditu lurralde historiakoak ya tenemos aquí un primer destino de los recursos disponibles

el consejo de gobierno aprobó el martes un proyecto de ley que

de la paga extra que quedaba pendiente del año dos mil doce la medida tendrá un impacto presupuestario que ronda en torno a los cincuenta millónes de euros y el presente ejercicio diecisiete a la mayor disponibilidad

una previsión de cierre de recaudación por tributos concertados que supera la inicialmente presupuestada estamos en este sentido valorando poder desarrollar una serie de actuaciones en ámbitos como las infraestructuras o en la educación mediante el adelanto al dos mil diecisiete

futuros y por último el gobierno tampoco descarta incurrir en un menor endeudamiento de manera que la carga financiera en los próximos años sea más llevadera y tengamos un margen adicional

algunas de las materias pero creo que son demasiado técnicas como para que entremos hoy aquí a concreciones ya entraremos usted y yo en otra conversación sí

algunas inversiones porque no es eso lo que usted ha venido diciendo en los últimos días desde que se hizo el consejo vasco de finanzas usted ponía sobre la mesa constantemente el tema de la reducción del déficit final del dos mil diecisiete estaba hablando constantemente del endeudamiento y usted hoy me lo ha vuelto a poner encima de la mesa parece que de momento lo que tienen claro es que van a gastar cincuenta millónes de euros

porque son ustedes de las pocas administraciones que todavía quedaban pendientes de hacer esa liquidación con trabajadores públicos bienvenido sea pero sí es cierto

que el resto de grupos también pudiéramos saberlo más allá de aquellos que le apoyan presupuestariamente porque no es lo mismo iniciar inversiones en el último trimestre del año que usted va a incorporar sin duda alguna

lo que tendrá que hacer que dejarlos para futuros ejercicios porque cuando usted me habla del tema de la deuda

yo insisto la deuda del gobierno vasco no está en unas cantidades tan preocupantes como las que tiene el gobierno español y ustedes cumplen a rajatabla las limitaciones que les impone el gobierno español e insisto estos cuatrocientos o los trescientos y pico

parecidas esas cantidades no son del ejercicio dos mil diecisiete y usted lo sabe como yo no son cantidades generadas en el dos mil diecisiete son cantidades generadas

algo más de lo que ustedes ponen sobre la mesa si tienen que negociar negocien corresponda pero sí creo que existe un margen porque usted era quien pedía más ingresos públicos

tiene ahora mismo sobre la mesa una oportunidad única y extraordinaria como usted puede reconocer y seguro que lo reconocerá es única y extraordinaria puntual

para reforzar esas políticas públicas que desde nuestro grupo creemos que están debilitadas desde hace muchos años y para eso lo único que hace falta es voluntad política y nosotros

pueden ser diferentes aunque sinceramente creo que las suyas y las nuestras pueden no ser tanto

la que usted quiere hacernos ver hoy efectivamente en el año dos mil diecisiete por ese acuerdo es un año

y por eso el gobierno precisamente por el acuerdo que alcanzamos cuenta con recursos excepcionales recursos que por otra parte no se pueden aplicar

lo que se tenga que hacer con esos recursos adicionales sea algo que haya que hacer este mismo año y además tendrían que ser gastos no recurrentes porque en la medida que sean gastos recurrentes los que anticipamos cada año estaríamos generando

estamos trabajando es verdad que como decía que esta cuestión seguramente desde el punto de vista técnico tiene muchas complejidades y yo estoy dispuesto a explicarle

lo que haga falta para clarificar porque creo que es un tema que hay que definitivamente clarificar pero en todo caso tenemos que ser realistas yo creo que con nuestra gestión

y hacer las cosas como se deben hacer eskerrik asko

señor retortillo durante los meses de julio y agosto de dos mil diecisiete el fenómeno del turismo y sus consecuencias ocuparon la atención de los medios de comunicación

no todos ellos adecuados ni acertados los cuales han puesto de relieve la necesidad de abordar este debate en profundidad es decir un debate fundado en el análisis

altisonantes y titulares simplistas en las ciudades vascas de forma evidente en los cascos históricos de donosti de bilbao y en menor medida en gasteiz

e imprevistas de la apuesta decidida de las instituciones vascas por vender euskadi como un territorio de oportunidad en el mercado global de los operadores turísticos un mercado

se ofrecen como un producto que busca atraer inversiones que se traducen en el aumento de los flujos turísticos hacia el territorio ofertado

con términos como turismofobia nacionalista o radical y reducir el debate a la dicotomía

antes que afrontar la responsabilidad de tomar medidas eficaces para combatir las consecuencias negativas de una gestión deficiente y de un fenómeno que como es el turismo es sin duda global desde elkarrekin podemos ya hemos señalado en anteriores intervenciones que el debate de modelo turístico es también el debate de modelo de ciudad

y sobre el modelo de planificación urbanística un modelo que supone el seis por ciento

pero que cuando fomenta flujos turísticos de manera descontrolada tienen

y tenemos que reconocerlo reconocemos por supuesto los aspectos positivos que tiene el turismo y que aporta a la sociedad el turismo en sí tampoco puede ser un problema

en todo caso lo serán el modelo de turismo de agricultura o de industria para intentar afinar más

ya sea de pino de fábricas de tornillos o de bares de pinchos para turistas más aún cuando este monocultivo

y u omisión por parte de quienes mandan más preocupados por atender las exigencias de los lobbies que las necesidades y derechos de la población el problema

que unos son más conscientes y respetuosos que otros pero en eso la verdad no se diferencian en absoluto de las personas que viven en los municipios vascos además salvo quienes se desplazan por pura supervivencia

incluidos los que preferimos vernos a nosotras mismas como viajeras las consecuencias que se derivan del aumento en el número de visitantes algunos de los cuales son turistas en su propia casa son ahora un motivo lógico de preocupación la condición turista

es causa y efecto de cambios en el paisaje de ciudades y pueblos para empezar el turista es un efecto y en gran medida

turística internacional que favorece el consumo rápido de los lugares visitados en detrimento de otras fórmulas menos rentables el incremento de la tasa de beneficio

dogma que en el caso que nos ocupa implica un modo de consumir el territorio cuyas consecuencias sociales y culturales y por supuesto medioambientales han sido objeto de análisis académicos y protestas sociales desde hace tiempo consecuencias que olvidan a sabiendas los defensores y apologetas del turismo en euskadi con el gobierno vasco a la cabeza como un nuevo maná económico del que brotará progreso y felicidad para todas olvidando de paso

que realmente diseñan el futuro en los países de europa si algo da dinero es intocable si algo da mucho dinero es sagrado así funciona la lógica neoliberal

que fiar el futuro al incremento perpetuo y descontrolado del número de turistas es insostenible y no solo lo décimos nosotras

del trece de septiembre en el que literalmente dice el modelo turístico se debe replantear por completo el crecimiento sostenible y ordenado es sin duda positivo

pero un crecimiento descontrolado no lo es y desafortunadamente en el mundo desarrollado cada vez hay más ejemplos como los de barcelona y venecia incluso

puede llegar a serlo también responsables políticos que pertenecen a los partidos y conforman el gobierno vasco han incidido en esta idea

el doce de agosto que donostia debe afrontar las consecuencias negativas del turismo

alcalde la capital guipuzcoana durante veinte años el pasado nueve de junio en unas jornadas para repensar el modelo turístico

que con el modelo turístico actual de san sebastián se puede morir de éxito si no se toman medidas y es que el problema no son tanto las incomodidades que se prolongan durante cuatro o cinco meses por una gran afluencia de visitantes lo más grave es la expulsión de la gente hacia la periferia así como los bajos salarios además

en una rueda de prensa concedida este verano declaró que la parte vieja se está convirtiendo

el modelo turístico ninguno de los citados anteriormente

de turismofobia o de radicalidad y podríamos citar las decenas de protestas y manifestaciones pacíficas en las capitales vascas reclamando un cambio en las políticas turísticas y señalando el fenómeno de la turistificación y su impacto negativo en algunos puntos de euskadi

y de mirar para otro lado hay vecinas de los cascos históricos

que ven afectada su vida cotidiana cada vez que bajan a comprar el pan se enfrentan a un cambio radical en sus calles y barrios

hacia donde miren habrá turistas muchos turistas tanto que a veces no se puede atravesar ciertas calles sino también por la paulatina desaparición del tejido comercial tradicional y local sustituido muchas veces por franquicias con el consecuente encarecimiento de la cesta de la compra que eso supone para las vecinas sin olvidarnos de la precarización de las y los trabajadores del sector y de la destrucción del patrimonio material e inmaterial

aunque a ustedes les parezca exagerada la realidad es que la búsqueda indiscriminada del aumento de turistas es causa directa

en los cascos históricos de las capitales vascas y que como ya hemos dicho afectan a la vida cotidiana de vecinas y vecinos pueden ustedes constatar también

como consecuencia de la irrupción de los pisos turísticos

a turistas a precios desorbitados lo hemos dicho muchas veces hay que regular y controlar la actividad con medidas efectivas que ya se aplican en otras ciudades

es normal que las vecinas protesten y es nuestra obligación escucharlas y tratar de ofrecer alternativas señor retortillo siguen ustedes y su departamento

a reconocer la necesidad de un cambio en el modelo turístico de euskadi y en tomar medidas que aborden los impactos y consecuencias del turismo los positivos
los negativos y los previstos y los imprevistos mila esker eskerrik asko

señora garcía empezaré por darle las gracias

quiero decir que la interpelación me lleva a un debate que ya hemos tenido en el que usted expuso

los mismos argumentos y en el que creo que mi posición también es conocida

de aquel debate que se produjo hace menos de tres semanas decía yo entonces literalmente que aquella comparecencia

a la imagen distorsionada que podía haberse dado de la actividad turística en euskadi a partir de lo que usted llama acontecimientos no siempre adecuados ni acertados que se habían producido en verano

de la razón por la que presenta la interpelación me dice que esos acontecimientos y el hecho de que aparecieran en los medios o que en los medios a partir de esos acontecimientos se planteara un debate público sobre el turismo es lo que refleja dice usted literalmente y lo ha repetido ahora

pone en relieve la necesidad de abordar este debate en profundidad es decir qué si algo no sale en los medios

o por otro lado todo aquello que sale en los medios es lo que debemos debatir yo discrepo de esa posición durante muchísimo tiempo

a problemas sociales que debían atenderse en el espacio público y desde luego en el debate político y lo mismo al contrario se han colocado señuelos y debates que no se correspondían con la realidad que eran debates artificiales pero

y entonces hablábamos de eso que nos marque la agenda ese tipo de acontecimientos respecto de cuáles son los problemas que tenemos

que discrepe en segundo lugar esta posición le lleva a inferir

que le vuelvo a negar aquí me dice usted que es evidente que las ciudades vascas sufren las consecuencias negativas del turismo las ciudades vascas

de esas ciudades le negué con datos en aquella comparecencia esa imagen que se pretende trasladar

básicamente de las capitales como capitales masificadas por el turismo y acogotadas por los problemas que ese turismo masificado produce como le decía niego y se lo negué entonces con datos

ahora aquí pero si quiere luego se los doy otra vez con datos que

la población ni en términos del número de plazas hoteleras por la población

el caso particular de donostia san sebastián que está por debajo en esos índices por ejemplo de ciudades como santander de ciudades como santiago de compostela

están masificadas solo desde ese punto de vista podríamos aceptar que san sebastián también está masificada

en relación a esto hay que distinguir entre los turistas y los excursionistas y son problemas diferentes respecto a las políticas del departamento le dije entonces y le repito ahora que el turismo en euskadi

que aparece en las políticas turísticas de euskadi hace mucho tiempo ni siquiera quería

presumir desde el punto de vista de mi acción política en el corto tiempo que llevo

y le dije entonces que la apuesta por la sostenibilidad precisamente en el caso del turismo en euskadi es previa a la asunción

por otras administraciones en euskadi es más la primera firma del compromiso por la sostenibilidad en la dirección en el diseño y en la gestión de las políticas turísticas por parte del departamento de turismo

una viceconsejería y por parte de su empresa pública basquetour era una apuesta que se había tomado incluso antes del compromiso que naciones unidas hace por los objetivos de desarrollo sostenible lo hace en abril y los compromisos de desarrollo sostenible

es de septiembre de dos mil dieciocho es una apuesta de largo recorrido que supuso de los ocho departamentos de entonces a seis departamentos en políticas de sostenibilidad dirigidas a turismo y que afortunadamente a partir también de esa clarificación de la agenda dos mil treinta y del compromiso del propio gobierno vasco

a la acción del conjunto de la administración pública vasca al menos en su nivel máximo de gobierno las políticas turísticas

el de la calidad y el de la profesionalización y el de la ordenación

ya le he dicho que es una apuesta de largo recorrido que está presente en multitud de acciones

dirigidos específicamente y desde hace años a fomentar buenas prácticas a fomentar el desarrollo tecnológico a desarrollar la calidad en los servicios turísticos que ofertamos en las empresas que se dedican

de ser la comunidad autónoma en españa que tiene el mayor número de certificaciones

turística en relación a la actividad turística de empresas en otras comunidades autónomas en ordenación la ley de turismo es del año pasado dónde no podía estar el debate sobre el modelo turístico si no era precisamente en el marco de elaboración de esa ley

en vigor y para la elaboración de esa ley no solamente fue un debate aquí entre sus señorías sino que se incorporó la participación de un montón de agentes

pero que fueron escuchados y hubo un debate entonces sobre el turismo no creo que pudiera plantearse un debate sobre una ley que además reformulaba

pionera en aquel momento para una comunidad en la que había tan poca actividad turística cuando se enfrenta por fin la necesidad de reforma de esa ley del noventa y cuatro parece un poco extraño que no se plantease la necesidad de debatir de hablar sobre el modelo turístico varias leyes e incluso la modificación de la ley anterior se refieren específicamente a la apuesta por un modelo turístico sostenible que se refleja después en sus políticas como resultado de todo ello cuando nosotros analizamos a los turistas nuestros turistas no se corresponden en absoluto no hablamos solamente de cifras

al tipo de turista al tipo si quiere usted de viajero que acude a esos destinos

lo que yo rechazo a esos destinos con los que parece que pretende identificarse al destino turístico euskadi no se parecen en nada

el turista que visita euskadi es distinto según el estudio de ibiltur entre las motivaciones principales del turista que llega a nuestro país la primera es la conocida como city breaks es decir que buscan el turismo

la segunda de ellas es la enogastronomía un veintiuno por ciento seguida de cultura y eventos

no se parece a ese tipo de turismo ni siquiera el perfil del turista como resultado de esas políticas turísticas como resultado de qué es lo que promocionamos qué tipo de turista buscamos

al perfil del turista de esos destinos masificados ahí es donde deberíamos observar también esa crítica que es lo que yo rechazo esa posición no de debate sobre el turismo que me parece muy interesante sobre todo porque efectivamente estamos viendo en el mundo como hay un cambio de pauta de uso del viaje en el mundo pero

no puede llevarnos de manera mecánica a identificar que eso es lo que nosotros tenemos porque no lo tenemos

como un destino masificado y perverso el turismo trae

porque nos ayuda a mirarnos de manera diferente trae beneficios a la economía local porque promociona productos de la economía local y además coincide con la propia estrategia

señor retortillo la verdad que usted ha hecho aquí

en que eso es una falacia absoluta eso no es real y en ningún caso además yo lo he dicho lo que he dicho y hemos dicho además en varias intervenciones ha sido que es a raíz de una serie de titulares y de un debate que a nosotras nos parece simplista y que a nosotras nos parece el que no es adecuado claro usted me habla de la ley de turismo de hace un año

no estaba en esta cámara aun así el modelo turístico

hay que hacerla pero no porque lo digan los medios de comunicación porque ya hablábamos en anteriores intervenciones de que por ejemplo había puntos de euskadi porque usted se empeña en decir que nosotras hablamos de una masificación conjunta en todo euskadi

hay puntos de euskadi que sí que están masificados y sobre todo hay puntos de euskadi que pueden estarlo en los próximos años

porque lo que queremos es prever no somos barcelona no somos venecia es verdad pero queremos prever eso entonces es evidente que los debates

no hemos dicho en ningún momento hablamos

lo que sucede con el turismo en euskadi y es verdad que nosotras

es una realidad aunque usted se empeñe en negarla nos parece además que no actuando contra los pisos turísticos ilegales o haciéndolo de manera tan tibia

tras reiteradas denuncias vecinales o aprobando normativas de terrazas que sacrifican el espacio público

se han quitado bancos públicos para que una cafetería pudiera poner sus mesas en la acera usted puede decir esta es su opinión sí pero es una opinión fundamentada

por qué iban a anunciar el alcalde eneko goia que la parte vieja será declarada en dos mil dieciocho

pues no será porque la asociación de vecinos y otros agentes no lo hayan venido advirtiendo

no se puede advertir sino como una aceptación más explícita que implícita de que como mínimo no se han tomado las medidas adecuadas mientras el pnv como cada vez que se encuentra ante una polémica ciudadana que no le gusta

un terreno en el que sin duda se encuentra mucho más cómodo desde las instituciones intentan tranquilizar a la población con mensajes que repiten aquí constantemente del tipo en euskadi el sector turístico aún tiene margen para el crecimiento

la percepción de que haya saturación o esto como ya le he dicho antes no es barcelona ni mallorca

ya ya lo sabemos y lo hacen a pesar de que saben que no es cierto saben además que decir estas cosas no alivia en absoluto la situación

o en sectores que por ejemplo ven que su derecho a acceder a una vivienda se recorta aún más porque los alquileres se disparan ni a las trabajadoras que es un tema del que usted no ha hecho ninguna mención

un turismo lo hemos dicho aquí muchas veces de calidad no lo es si no tiene empleos de calidad así las cosas no nos extrañaría nada que algunos prefieran jugar a la carta

a afrontar la responsabilidad de tomar medidas eficaces para combatir las consecuencias negativas de una gestión local deficiente le voy a dar datos según

con una oferta turística gigantesca en ese barrio se encuentran sesenta y dos

de esta manera el visitante podrá elegir entre doscientos ocho apartamentos turísticos

las cifras también indican que hay un establecimiento hostelero cada veintinueve habitantes sin embargo no es oro todo lo que reluce de acuerdo a un estudio efectuado por la organización vecinal al menos el ochenta y cuatro por ciento de la oferta pisos turísticos

es ilegal con estos datos a la vista los vecinos temen que este barrio acabe convertido en un parque temático en definitiva señor retortillo si no tomamos las medidas oportunas

traerá consecuencias negativas al sector turístico en euskadi más vale prevenir que seguir lamentándonos no es todo

se lo vengo diciendo ya hace unas cuantas intervenciones muchas gracias

eskerrik asko presidente andrea señora garcía me sorprende el dato que ha dado

pues peor que una ciudad del monopoly está llena de hoteles no puede ser un establecimiento hotelero cada veintinueve habitantes no puede ser tiene que haber querido decir otra cosa

en ese caso si fuera así efectivamente habría una saturación turística establecimiento hotelero insisto me dice

en ningún caso estaba en contra porque eso es un resultado de eso de los titulares simplistas de los que usted hablaba que enseguida apareció la etiqueta y no porqué se empezó a girar el debate en torno a esa etiqueta yo no he hablado en ningún momento de turismofobia y no voy a hablar de turismofobia porque no creo que hubiera turismofobia

dice las consecuencias previstas de la apuesta decidida de las instituciones vascas por vender euskadi como un territorio de oportunidad en el mercado global de los operadores turísticos

la llamada oferta cultural se ofrece como un producto que busca atraer inversiones esto no es que sea turismofobia lo que parece lo que parece respirar es rechazo del turismo que es una posición legítima políticamente

está bastante en contradicción con sus propias afirmaciones en la primera comparecencia parlamentaria que yo tuve en enero de este año no encaja muy bien lo que dijo entonces sobre el turismo con esta visión mercantilista etcétera que parece proyectar sobre la actividad turística

en otro tipo de actividades hay problemas en las ciudades por supuesto

son nuevos eso problemas no hay problemas por ejemplo decía usted con el alquiler

desgraciadamente no llevan presentes en este país dos tres cuatro o cinco años ni los del alquiler ni los de la propiedad de la vivienda ni los de la posibilidad que se independicen los jóvenes son

y tienen muchos otros elementos y eso también

de identificar el destino euskadi como un destino masificado como un destino sucio

es que también lo rechazo porque acaba identificándose problemas graves y problemas serios que sufren sectores segmentos de nuestra población acaban identificándose con una causa frívola es el turismo que el que acaba originando los precios elevados sí sí señora garcía

y no la inflexibilidad de la oferta el aumento de la demanda

la burbuja usted se enteraría que estalló la burbuja eso ha generado

añadidos a los que ya traíamos identificar como la causa de esos problemas y de otros problemas urbanos en la ciudad y específicamente en el casco viejo a mí me parece una frivolidad le diré más hemos hablado antes de la importancia que tiene para el debate público el hecho de que unas cosas lleguen

me gustaría que además de este debate que además de esta queja además de estas demandas ciudadanas otras muchas demandas que se producen

aunque estén en zonas más alejadas del centro también llegasen con esa facilidad a las portadas a lo mejor en ese caso las consideraríamos para el debate público

al debate sobre el turismo porque es verdad que la cultura de viaje ha cambiado ojo con un elemento positivo la democratización porque eso de que solamente solo viajen algunos yo tampoco estoy de acuerdo pero es verdad

pero para enfrentar ese debate no identifiquemos a euskadi

una y otra vez una y otra vez no identifiquemos a euskadi como un destino masificado en primer lugar no frivolicemos el debate público sobre problemas muy serios en segundo lugar y en tercer lugar planteemos el debate

como se ha planteado en otros momentos a mí lo que me llama la atención es que precisamente por esos acontecimientos que usted decía no todos acertados no todos justos

le demos la vuelta al debate sobre el turismo en euskadi y lo planteemos en términos negativos por qué porque el turismo es bueno para euskadi es bueno en sí mismo es bueno para otros sectores de actividad en euskadi y además favorece la necesaria estrategia de internacionalización

se ha cumplido el trámite preceptivo de reunir al consejo asesor de patrimonio arquitectónico monumental de euskadi monumentu ondarearen

para llevar a cabo la descatalogación del edificio del bellas artes de donostia tal y como prevé la ley de patrimonio cultural vasco en su artículo diecinueve punto uno eskerrik asko

a la descatalogación del palacio bellas artes de donostia y que para ello debía haber reunido preceptivamente el consejo asesor de patrimonio

como bien conoce porque se ha informado al respecto en varias ocasiones tanto en pleno como en comisión el gobierno vasco

el expediente para la inclusión del edificio bellas artes en el inventario general del patrimonio cultural vasco

a la orden de la consejera de educación política lingüística y cultura de marzo de dos mil quince

en una sentencia del año dos mil diecisiete el tribunal superior de justicia del país vasco

articulada por la propiedad y ha anulado la orden del departamento por lo tanto la retroacción del expediente supone la anulación de la orden es decir la orden no existe en el ordenamiento jurídico jurídicamente por tanto

no ha existido y el edificio en cuestión nunca ha estado catalogado no estando catalogado carece de aplicación el artículo diecinueve punto uno de la ley de patrimonio cultural por ello

cuatro de octubre de dos mil diecisiete que señala expresamente primero que se ejecute la sentencia número ciento noventa y seis barra dos mil diecisiete del tribunal superior de justicia del país vasco

articulada por sade y por lo tanto anula la resolución impugnada

segundo acuerda no inscribir el palacio bellas artes de san sebastián como bien cultural con la categoría de monumento en el inventario general del patrimonio cultural vasco

no se corresponde con la de los bienes de mayor relevancia o singularidad condición necesaria para su conservación a ultranza

respecto al procedimiento para descatalogar un bien cultural inventariado en la ley de patrimonio cultural vasco el artículo diecinueve punto uno que para dejar sin efecto la declaración deberá someterse a los mismos requisitos y trámites que para declararlo el bellas artes fue declarado bien cultural tras el informe positivo del consejo asesor del patrimonio arquitectónico monumental de euskadi

dicho consejo no se ha convocado para que se pronuncie al respecto según la información que nosotras tenemos

además el artículo diecinueve punto dos añade que se tendrá en cuenta lo dispuesto en los apartados dos y tres del artículo quince

el acto administrativo por el que se acuerde dejar sin efecto la calificación deberá ser motivado

la alteración de las condiciones que motivaron la calificación no podrá ser causa determinante a los efectos previstos en el apartado anterior si el nuevo estado en que se encuentra el bien afectado se debe al incumplimiento de las obligaciones exigidas por esta ley

con la inestimable ayuda de las instituciones vascas gobernadas

lleva años sin cumplir con sus obligaciones y ustedes les han permitido durante años incumplir con sus obligaciones recogidas en la ley

que ello ha ocasionado al edificio que ahora ponen a disposición de la misma propiedad para sus operaciones especulativas a ustedes la cultura vasca les importa solo si va unida a la chequera a grandes infraestructuras culturales con apellidos americanos

tampoco se ha hecho por parte del gobierno vasco la valoración económica

o de hecho cuando la rehabilitación del edificio supere en un cincuenta por ciento el importe de construirlo eso se llama valor de reposición por otra parte desde el punto de vista estrictamente político han incumplido ustedes

solicitando que se mantuviera la declaración de bien cultural del edificio y lo que es absolutamente vergonzoso se ha tomado el pelo a los ciudadanos que comparecieron en la comisión de cultura el nueve de octubre para defender su mantenimiento como bien cultural cuando la orden del consejero se había firmado cinco días antes

ni a la oposición ni a los ciudadanos comparecientes ustedes en este caso

que se ha reído de la ciudadanía de donostia de sus instituciones y de todas en general a la que ahora premian ofreciéndoles la posibilidad de hacer con el bellas artes lo que quieran queda retratada su política cultural señor zubiria

usted sabrá cuáles son los suyos mila esker eskerrik asko

señora garcía yo no me siento capaz de entrar en un debate jurídico con usted sobre esta cuestión los servicios jurídicos del gobierno se consideran que con la sentencia

a la situación anterior en la que el bien fue calificado o inventariado por lo tanto a partir de ahí tomamos las decisiones que debemos tomar la sentencia también dice

es una declaración que garantiza los derechos a la propiedad de ese edificio de una propiedad privada

solo pueden ser impedidos conforme a una declaración por parte de las administraciones públicas lo que supondría asumir una responsabilidad patrimonial de enorme cuantía para proteger sin exigir nada a cambio responsabilidad patrimonial que debería caer en un porcentaje elevado

la propiedad ha exigido al gobierno un importe de cinco millónes de euros dicho esto y teniendo en cuenta que estamos hablando de una propiedad privada entiende usted que debe concederse

que está por encima de su valor real nosotros entendemos que no y no debemos olvidar que el edificio en cuestión ya está protegido de forma suficiente

en el plan especial de protección del patrimonio urbanístico de donostia

a lo que el alcalde eneko goia señaló en este parlamento la semana pasada comparto con el señor alcalde de donostia que lo mejor para este caso es asegurar
protección básica al edificio bellas artes y compatibilizar esa protección con su uso eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

señor consejero no es la primera vez que en este parlamento se pone en evidencia el uso político

no es la primera vez que se pone en solfa la objetividad y la imparcialidad de etb

en la ley de constitución del ente de respeto al pluralismo político y a la promoción de los valores cívicos de convivencia consagrados en la constitución y el estatuto esa utilización política

ha emitido etb desde septiembre y más intensamente desde el día uno de octubre publirreportajes diseñados al servicio de un posicionamiento político

y de junqueras del posicionamiento político del proyecto independentista usted cree señor consejero que cuantitativamente y cualitativamente ha sido objetivo y proporcionado el tratamiento que sobre lo sucedido en cataluña se ha dado en etb

los nuevos que se han diseñado así como el despliegue de enviados a cataluña pero le quiero preguntar usted cree señor consejero

ese profuso despliegue se ha dado en otros acontecimientos con una repercusión pública y mediática objetivamente mayor y cualitativamente señor zupiria cree que el tratamiento que se ha hecho de los sucedido en cataluña ha sido el correcto que se ha informado objetivamente

tendencioso cree de verdad que los criterios que han imperado han sido criterios informativos o por contra se ha impuesto el criterio del servicio a un fin político concreto

presidente andrea señora representante del partido popular creo que es costumbre en los gobiernos democráticos

sobre la línea editorial o la cobertura informativa que estos medios ofrecen a los acontecimientos informativos sean estos medios públicos o privados

que usted no comparta esa opinión y se sienta más cercana a otros gobiernos que sí lo hacen este gobierno no establece criterios informativos y este gobierno mantiene una actitud de respeto hacia el criterio profesional y las decisiones editoriales de cuantos profesionales y responsables

insisto tanto en los medios públicos como en los privados en lo que respecta a e i te be este gobierno respeta la autonomía de los profesionales y directivos responsables de tomar decisiones editoriales y respeta de la misma manera la autonomía

de los órganos que la ley ha creado para el control de e i te be como son su consejo de administración y la comisión parlamentaria de control de e i te be órganos de los que usted es miembro y donde puede ejercer su legítimo derecho de control y censura

en las decisiones editoriales de e i te be gracias eskerrik asko

señor consejero el gobierno vasco tiene un contrato programa con e i te be que es el que fundamentalmente financia e i te be y en virtud de ese contrato programa se tiene que cumplir una serie de fines y que el gobierno vasco tiene que velar porque esos fines se cumplen y señor consejero la sociedad vasca tiene que

porque cómo se va a ver reflejada si lo que piensa es una cosa y lo que se emite en etb es otra la sociedad vasca no es mayoritariamente independentista así lo dice el euskobarometro que dice que el independentismo tiene un apoyo alrededor del treinta por ciento el deustobarómetro dice que se queda en un dieciséis por ciento pero es que es más

e i te be decía que el setenta por ciento de los vascos no querían que el proceso catalán se repitiese en euskadi y ello a pesar de la imagen que etb ha dado de lo sucedido en cataluña porque ha dado una imagen idílica una imagen romántica intentando vender las bondades del proceso catalán dando profusión de imágenes de los independentistas y acallando la postura de aquellos

en un momento en el que como digo el independentismo es bajo sin embargo se trata desde e i te be de alimentar de insuflar y de engordar ese sentimiento

todo vale hacer nuevos programas hacer nueve horas de emisión sobre cataluña llevar

del mismo signo e incluso hacer preguntas bochornosas como esta

más de once millónes de euros al mes a los vascos se pueden hacer preguntas bochornosas como esta señor zubiria esto no es amarillismo político esto es adoctrinamiento y los vascos no nos merecemos

nos merecemos una televisión pública objetiva veraz y que respete el pluralismo político y etb en este momento
de ser eso isiltasuna y usted tiene responsabilidad en ello eskerrik asko

y he entendido el ambiente de dificultad en el que se desenvuelven los profesionales de la información y la comunicación

y además se encuentran expuestos a la crítica política no siempre bien intencionada conozco y entiendo esa dificultad que se produce tanto en e i te be como otros grupos y medios de comunicación vascos

les exige a todos que sean honestos y veraces y que se esfuercen en recabar opiniones y puntos de vista diferentes en torno a las cuestiones que la actualidad plantea están obligados además todos ellos a responder a la línea editorial que marcan sus propietarios

sus consejos de administración y sus juntas de accionistas y en el caso de los medios públicos lo deben de hacer de acuerdo a la pluralidad representada en sus órganos de control

en nuestra sociedad y en esta cámara y los responsables de e i te be como los de otros medios de comunicación desempeñan su labor en este contexto

la realidad no es única es percibida de forma diferente por unos y otros y es interpretada de acuerdo a una diversidad de puntos de vista que existen en la sociedad sería recomendable que todos los medios de comunicación sean conscientes de esa pluralidad

y la recogieran en sus emisiones pero además creo que la mera existencia de e i te be es una garantía de esa pluralidad

no podría escuchar muchas de las expresiones que esa pluralidad tiene si e i te be no existiera porque la verdad es que a menudo no hay ni donde verlas